bueno en primer lugar nuestro más sincero agradecimiento

bidebieta madres padres vecinos vecinas alumnado profesorado por el esfuerzo

en el pleno de hoy dejando sus trabajos solicitando para estar hoy con nosotros nuestro más sincero agradecimiento por toda la pelea que estáis realizando por la escuela de barrio por el barrio

y todos sin dejar a nadie atrás comprometidas y luchando por esos barrios que no aparecen en las fotos que no aparecen en los trípticos turísticos de las ciudades

gracias a vosotros hemos llegado hasta aquí y desde luego seguiremos peleando para conseguir la escuela pública que se merece bidebieta

eta komunitarioan eragingo du el posible cierre y no son palabras mías no este año parece que este año no va a ser pero ya veremos más adelante de un centro educativo público en euskadi en este caso en donostia

no es únicamente un asunto con posibles consecuencias en el conjunto del sistema educativo vasco que también porque además supone una nueva

de todo un barrio a la vida de las personas que viven en ese barrio porque podríamos

a debates sobre el número de matrículas suficientes para mantener un centro abierto o no de las razones que llevan a ese número bajo de matrículas pero bueno en realidad lo que a nosotras y a nosotros nos importa es que lo que estamos hablando es de la pérdida de un servicio o de la posible pérdida de un servicio público esencial porque podríamos hablar de más casos

dejar a un barrio huérfano de escuela pública y supone además como se ha comentado anteriormente dejar como única vía

en otros barrios de euskadi única vía para las familias la escuela privada

porque ahora parece que sigue abierto pero vamos a aquellas declaraciones del mes de noviembre esas intenciones

a cerrar eso es serio qué ha cambiado de noviembre al día de hoy igual ha cambiado un barrio movilizado un barrio comprometido

vaya dando anuncios en noviembre y en enero venga a decirnos que sigue abierto nos felicitamos claro que sí pero es serio esa actitud el gobierno justificaba y decía que el cierre del centro bueno pues tenía varios argumentos que si

poca matricula podrían ser causas que podríamos llamarle

técnicamente serian razones técnicas porque lo que habría que analizar es de dónde venimos por qué se da esta situación

de barrios porque no es el único barrio de euskadi en el que se está produciendo y por eso no nos gustaría quedarnos con estas únicamente con estas razones técnicas sino que ir a la verdadera esencia del problema a las razones

que la educación pública vaya desgraciadamente hacía abajo

de un día para otro de la noche a la mañana no estas intenciones del gobierno yo creo que no estarían

planificadas quiero pensarlo porque de lo contrario también sería

y seguramente también existan diversas razones por las que la matricula baje porque las familias

educativos esa tan cacareada y tan falsa de elección que tenemos en este país porque esas declaraciones del gobierno de noviembre

de elección de centro a las familias poner a las familias en la situación

en serio piensan señores y señoras del gobierno que eso es libertad de elección de centro pues yo

alejado de esa situación una interpelación de euskal herria bildu en diciembre y el gobierno tendía la mano en la respuesta a esa interpelación a la elaboración de un proyecto educativo innovador

con su centro sin embargo también en nuestras primeras enmiendas al margen de la transacción que hemos

necesario que sin duda era un factor que iba a ayudar y que iba a redundar en la calidad de la oferta educativa

no solo ese era el paso que necesitábamos eh bilduko mozioaren lehenengo

hemos concretado en la transacción que hemos presentado en el día de hoy hemos concentrado algo que pensábamos que iba a ser de común acuerdo de todos los grupos pensábamos sinceramente

y realista en nuestra opinión claro con compromisos concretos que es lo que echamos de menos en las propuestas que nos han

al gobierno con compromisos concretos para el gobierno no solo para el centro no solo para la comunidad educativa pero de nuevo nos encontramos que no hay compromisos concretos del departamento de educación más allá de mantener la matricula

en etb faltaría menos una mala gestión de ese anuncio de noviembre y ahora parece que sí que se mantiene abierto y vuelvo a decir que si es serio andar con este tipo de situaciones porque a nosotros nos hace pensar en junio qué vamos a tener noticias espero que solo sean buenas y en dos mil diecinueve tendremos noticias también porque espero de nuevo

pero si no se toman medidas mañana podrá ser otro centro educativo o hay compromisos o nosotros y nosotras no daremos ningún cheque en blanco

insuficientes o las matriculas suficientes para tener un centro abierto el problema es que se está dejando morir conscientemente y decididamente a la escuela

moción de bildu sobre el proyecto del departamento de educación para el instituto

contextualizando un poco y como ya conocemos el instituto de bidebieta de educación secundaria obligatoria ha tenido una trayectoria de subidas y bajadas

en el que alcanzaba una extensa matriculación de alumnos y alumnas se fundó en mil novecientos setenta y seis cuando la zona estaba en plena expansión y el baby boom hizo que se demandará más plazas educativas e incluso llego a tener

esa trayectoria por la que ha pasado este instituto y esa disminución de matriculaciones se debe a varios factores en gran medida que el mayor número de las matriculas

concretamente esta en trintxerpe ofreciendo el itinerario completo desde los dos a los dieciséis años una vez que el proyecto de eso para karmengo ama se realizó este

fuente de alumnos para el instituto de bidebieta hasta entonces la alternativa más cercana que tenían los estudiantes del municipio era acudir a bidebieta si sus familias querían optar por la enseñanza pública por otro lado nos encontramos con el colegio público de mendiola un colegio de educación primaria con muy pocas matriculaciones y por lo tanto cuando los alumnos cumplen la edad para pasar a la eso y matricularse en el instituto el cupo de alumnos

es muy bajo no llegan actualmente ni a una media de diez alumnos por nivel el catorce de diciembre del diecisiete ya se ha hecho mención aquí se le interpeló a la consejera de educación sobre ese mismo tema en dicha interpelación se explicó la situación del instituto bidebieta y cito que había llevado a cabo varias actuaciones

teniendo en cuenta que las matriculas habían venido disminuyendo año

se intentó reforzar un proyecto para que el alumnado no procediera únicamente de la escolarización fuera de plazo que parece que es a lo que estaba abocado

con el fin de buscar y encontrar una solución para darle continuidad al centro la consejera de educación en esa comparecencia asumió un compromiso que a nosotros nos parece muy importante

por buscar alternativas antes de proceder a ningún cierre nuestro grupo se quiere quedar con eso con buscar soluciones factibles para el instituto de bidebieta para que pueda seguir ofreciendo una educación pública vasca hasta aquí el diagnóstico es compartido prácticamente por todos los grupos políticos y creemos

en la comparecencia en el pleno de control de diciembre abre una ventana de oportunidad que creo que debemos de valorar positivamente y que todos debemos de aprovechar

un acuerdo unánime o casi unánime en este punto porque el diagnostico se comparte y probablemente haya

exigencia de compromisos por la otra pero creo que existe un cauce central importantísimo que debiéramos de seguir explorando entre los grupos políticos y con el departamento de educación

de la escuela pública en ese barrio y todos coincidimos en que hay que hacer los esfuerzos necesarios junto con la comunidad educativa para explorar todas las posibilidades que consigan mantener

en otro sentido el ayuntamiento de san sebastián en el pleno del día veinte de diciembre aprobó ya una enmienda presentada por los grupos nacionalista y socialista

el pleno del ayuntamiento de donostia solicita al departamento de educación y universidades del gobierno vasco analizar con la comunidad educativa del instituto de bidebieta el diseño del proyecto educativo que responda adecuadamente a las necesidades formativas

insta al gobierno vasco a que le mantenga informado de cualquier modificación sustancial

que se imparten en la ciudad por lo tanto existe también de forma constatable una preocupación también en la ciudad de san sebastián por el futuro

es imprescindible que el diseño de un proyecto estratégico para esta comunidad educativa porque el cierre de un colegio público nunca es una buena noticia ni para nosotros

por ello hay que trabajar entre todos para que eso no pase nunca porque además en ese barrio existen tres colegios concertados sostenidos con fondos públicos

como representantes públicos es mantener abierto el instituto público el proyecto tiene que ser inclusivo

de la comunidad educativa del instituto de bidebieta teniendo en cuenta a los vecinos padres madres alumnos y alumnas profesores y profesoras a la dirección del centro en definitiva a todos los agentes educativos consiguiendo de esa forma lo que todos

y aumenten las matrículas el proyecto debe ser cohesionador

están con ganas de trabajar y con sacar este proyecto adelante un proyecto que garantice las necesidades de escolarización y que garantice el derecho de elección de los padres y madres y el principio

vuelvo a decir lamento que no haya sido posible alcanzar ese acuerdo pero me quiero quedar con la parte positiva es que todos compartimos el diagnóstico y se ha conseguido

un intenso trabajo por delante grupos políticos comunidad educativa y el departamento para que esto no sea simplemente flor de un día si no que la situación del centro se consolide

analizar todas las posibilidades a pesar de que conozcamos las dificultades objetivas que tiene esta labor tal y como ya he referido anteriormente pero

es absolutamente imprescindible la participación de todos los agentes que conforman el centro no solamente de la administración se precisa impulsar un proyecto estratégico junto con la comunidad educativa que establezca la dirección a llevar por el instituto y se convierta en atractivo para las familias también para los profesores

en todos estos últimos años tanto en lo que se refiere a la cantidad de profesores

y se han analizado distintas opciones desde la revisión del mapa escolar que no es idea ni iniciativa

mejoras en la administración interna o la creación de una oferta atractiva entre otras es decir

porque es evidente que el barrio de bidebieta merece una escuela pública de calidad y para ello es esencial la participación de las familias

que desde el departamento vamos a apoyar y poner a disposición todos los medios necesarios para que los centros públicos puedan contar con proyectos adecuados que permitan garantizar la oferta educativa haciendo especial esfuerzo en aquellos que se hallan en situaciones más adversas

en nuestro grupo esta petición y las enmiendas de las que hemos tratado y les voy a decir

una a nivel del caso concreto de bidebieta y otro a nivel más general en lo que se refiere a educación vamos a ver el caso de bidebieta desde

estancias especialmente en el ayuntamiento siempre apoyado la causa de bidebieta pero en este caso concreto al ver los distintos documentos que están sobre la mesa la frustración viene de que en lo fundamental

estamos de acuerdo qué necesita bidebieta bidebieta necesita que siga abierta la matriculación para que el proyecto siga adelante

y está el compromiso de la señora consejera cuál es la segunda cosa que necesita bidebieta tener educativo que es cierto un nuevo proyecto educativo un nuevo proyecto que contemple el futuro de la entidad y la forma como se va a proporcionar educación eso es cierto

educativa pero también es cierto que se necesita apoyo ayuda del departamento pongamos el énfasis en que

que yo creo que no es correcto o pongamos el énfasis en que es misión de la comunidad educativa con ayuda del parlamento que yo creo que es lo correcto en este segundo punto también hay acuerdo en todas las partes

necesita inversiones inversiones para poder ofrecer un escenario digno y en esta tercera cosa también estamos todos de acuerdo entonces lo que yo no entiendo

con los que se ponían sobre la mesa entonces la frustración viene de que estando de acuerdo en lo que verdaderamente

y sabiendo porque creo que todos sabemos que si alguien se beneficiaria de una unanimidad en este punto es la comunidad escolar

no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo nosotros estábamos dispuestos a perder

sobre todo lo que es la parte teórica y la parte expositiva porque es que aquí nos han resucitado políticamente

que ustedes me dirán qué tienen que ver en esta historia

del gobierno popular estamos dispuestos a dejarnos en la gatera cosas con las que no estaríamos de acuerdo

en lo que todos estamos de acuerdo nosotros lo suscribimos esos tres puntos y por qué no se llega a un acuerdo pues la verdad por por énfasis en unos puntos

porque esto ha acabado siendo un asunto de confianza hay un grupo de la cámara que tiene confianza en los compromisos adoptados

por la consejera y hay otro grupo que no tiene confianza y la verdad es que es bastante triste que por una cuestión de confianza que al final casi es institucional pero casi casi es personal

de esta cámara detrás de las tres cosas que necesita matricula proyecto e inversiones con las que todos estamos de acuerdo

a nivel de este ejemplo concreto pero luego se produce también en nuestro grupo una frustración más general que es la frustración política

y social incluso social de cómo estamos encaminando todo el proyecto de educación el proyecto educativo de euskadi

podemos actuar a salto de mata a encontrarnos con un problema proponer una solución enfrentarnos a unas protestas retirar esa solución

por eso nosotros reiteramos aquí nuestra petición de que hagamos le pedimos a la consejería de educación que lo lidere pero necesitamos necesitamos un estudio a diez quince años de a dónde vamos en la educación

pero vamos para nosotros sería el fundamento

diez o quince años tenemos problemas

tenemos problemas de un alto número de estudiantes de culturas foráneas tenemos

la eterna el eterno falso antagonismo entre escuela pública y escuela concertada y por qué digo que es falso es falso porque no hay verdadera libertad de elección y eso yo lo suscribo con los que lo han dicho aquí

si un padre verdaderamente quiere o una madre lógicamente si los padres quieren

salga sabiendo inglés y en la pública no se ofrece un nivel suficiente de enseñanza

si una persona quiere un cierto enfoque a la educación que reciben sus hijos por ejemplo

reúne bajo su manto pero no puede pagar esas cuotas aunque sean voluntarias pero no las puede pagar

exige igualdad de condiciones igualdad de condiciones y tengo que reconocer que no se dan ni a favor de la escuela pública ni a favor de la escuela concertada todo eso lo tenemos que estudiar en un plan a diez o quince años

y que me temo que vamos a seguir teniendo cada vez que venga un tema de estos de y perdonen la expresión asalto de mata hay un problema lo intento arreglar la comunidad escolar protesta me echo para tras propongo otro

pido disculpas a los asistentes de bidebieta por haberme ocupado también de esta otra parte que no es exactamente su problema pero créanme

el actuar a salto de mata pero vuelvo a repetir todos coincidimos en lo mismo en que las matriculas tienen que permanecer abiertas para que

el centro en que se necesita un proyecto de centro que lo tienen que liderar ustedes y el tercer punto es que se necesitan inversiones que ha comprometido la consejera de educación entonces como consuelo les voy a decir que salga el documento que salga

porque cualquiera de los dos documentos se reafirman

que son la primera necesidad que tienen ustedes o sea que hubiera preferido unanimidad pero salga lo que salga sus necesidades quedan cubiertas
por ambos documentos eskerrik asko de bengoechea andrea erantzunen txandara pasatuz

y me vuelve a pasar una y otra vez con las palabras que ha comentado y yo creo que además ha dado en el clavo cuando ha mencionado la existencia de esos tres colegios concertados privados

y creo que puede explicar mucho de la situación que está viviendo bidebieta y que están viviendo otros muchos centros públicos en euskadi

zergatik fenomeno metereologiko arraro batengatik yo creo que no cuela

beste konpromiso zehatz batzuk behar dira porque se decía ahora en esta euskadi

que se ve tanto en esta euskadi que se ve tanto hay una euskadi también fuera

desigualdad sangrante que no lo décimos nosotros los datos están encima de la mesa tenemos este caso pero tenemos otros muchos aquí mismo en gasteiz en bilbao y en otras grandes ciudades y también por cierto pueblos

de la escuela pública y la escuela pública es fundamental una escuela además para todas especialmente además comprometida con las más

animo zuen borrokan nos vais a tener a vuestro lado vamos a estar vigilando que no solo sea este año que sea un compromiso

con proyecto educativo un compromiso con infraestructuras porque sino no vamos a poder garantizar ese futuro que tanto se merece no solo bidebieta pero también

señora bengoechea si me permite voy a empezar por usted ha hablado usted de que ha faltado confianza

pero me temo después de observar

la performance de la señora ubera que

que ante cualquier otra cosa nik uste gaurkoan ubera andrea tokiz

bakoitza izan dadila egin duenaren jabe preguntaba usted qué ha cambiado

yo creo que cambiar no ha cambiado gran cosa lo que hay es un trabajo interno

del problema existente en bidebieta no porque no existía concienciación en noviembre sino porque los datos decían que no podíamos no podíamos con los datos fríos decían que ante una previsión de diez se necesitaban diecisiete para conformar un grupo de

qué ha cambiado el trabajo interno y sí para nosotros es clave ese proyecto educativo

de aquí a septiembre vendrán las inversiones los servicios y toda clase de mejoras necesarias

bueno lo último que quiero es aparecer aquí como

hacer reproches a todos no digo

el sentimiento de nuestro grupo y la verdad

a tragarnos muchos sapos para llegar a un consenso pero imagínense qué difícil

es llegar a consensos cuando nos encontramos

conspiraciones y declaraciones conspiranoicas a ver yo no me puedo creer

que el gobierno vasco tenga un plan diabólico para ir cerrando escuelas públicas para potenciar

yo creo que en un arrebato de conspiranoia nos ha dicho el señor martínez no

a la escuela pública más dinero que cualquier otra comunidad en españa

y habría que hacerlo de otra manera y desde luego si algo creemos nosotros que tiene capacidad de mejora es el departamento de educación porque no nos luce ni en nuestra opinión se llegan a los objetivos que se deben llegar pero de ahí a suponer que hay una conspiración

y luego por supuesto lo que yo nunca diría tampoco

cada uno que haga lo que quiera ni soy yo quien para ir repartiendo carnets de que unos lo hacen bien y otro mal pero sí que digo lo que a nuestro grupo le parece o sea calificar de performance el trabajo de una diputada

creo todos tienen mi confianza en que son grandes trabajadores pero les voy a decir

que nos castiga proporcionándonos trabajos a los demás

entonces ahora ustedes comprenderán porqué no llegamos a un consenso verdad lo comprenderán pero yo les vuelvo a decir lo mismo salga lo que salga

salga lo que salga sus tres reivindicaciones básicas están garantizadas y señora

vamos a ver yo no creo en conspiranoias pero sí creo

que pertenece a nuestra cultura y a nuestra cultura humanística aunque tenga una fuente religiosa y es un dicho por sus hechos los conoceréis tenemos hasta septiembre para verdaderamente conocer por los hechos

ni las conspiranoias tipo el de cuarto milenio

hasta septiembre tenemos para aplicar esa máxima que está en nuestra cultura por sus hechos los conoceréis muchas gracias eskerrik asko

como todas saben el próximo veintidós de febrero es el día internacional de la igualdad

parece mentira pero en dos mil dieciocho seguimos necesitando un día internacional en el calendario para recordarnos especialmente que las mujeres y los hombres deberíamos cobrar lo mismo por el mismo trabajo

dudas de la existencia de esta desigualdad injustificable tenemos algunos datos el propio gobierno vasco informaba hace un año que la diferencia salarial

euros anuales y la ganancia media anual por persona trabajadora en la comunidad autónoma vasca es de treinta y uno mil doscientos setenta y uno euros en los hombres

en las mujeres las fuentes de estos datos es la encuesta estructural salarial del inem es un tema complejo al final de mes

nos llevamos un salario diferente y eso hace que nosotras en el día a día

también que nuestras prestaciones por desempleo o nuestras pensiones por jubilación

mucho más bajas nuestros salarios diferentes son también consecuencia de otras desigualdades por ejemplo el acceso desigual a trabajos

a turnos nocturnos a viajes y a pluses casi siempre somos nosotras las que no podemos porque tenemos que cuidar las que pedimos las excedencias o las jornadas parciales

y siempre somos nosotras las que tenemos un techo de cristal en algunos otros países le llaman suelo pegajoso y es tan pegajoso que no podemos seguir subiendo

todos estos obstáculos que tenemos para que no podamos desarrollar nuestras carreras profesionales en definitiva que pasamos raya y al final del año las mujeres en euskadi tenemos una media de siete mil cuatrocientos ochenta y nueve euros

en relación a este tema hemos traído aquí diferentes iniciativas en septiembre de dos mil diecisiete elkarrekin podemos registraba esta proposición no de ley que hoy estamos aquí debatiendo un mes después en octubre la formación confederal de unidos podemos en comú

una ley que pretende contribuir a finalizar con la discriminación retributiva

y que supondrá una mayor transparencia por parte de las empresas que permita detectar y corregir esta desigualdad

puesto que como ya hemos mencionado hay diversos factores para detectar la desigualdad en el ámbito laboral

que nos llevamos las mujeres a casa veremos qué pasa en el congreso aunque mucho nos tememos que puede ser difícil que prospere lo digo por lo de la mal frase con la que luego se ha corregido el señor rajoy que nos decía que la brecha salarial no es un asunto en el que tenga o deba intervenir un gobierno esta semana después de toda la presión social y

porque esta situación injusta que afecta a la mitad de la población exige una intervención más clara de los gobiernos de todos los gobiernos y porque además la comisión europea entre otros así lo establece por eso elkarrekin podemos trae esta iniciativa pongamos en marcha

la comisión europea en dos mil catorce informaba que las mujeres de la unión europea ganan como media

la misma comisión decía que hasta ahora solo se ha reducido a un ritmo mucho más lento muy lento ante manifestaban el compromiso de la comisión en favor de una firme movilización de todos los instrumentos legislativos y no legislativos para reducir la diferencia de retribución

la recomendación de la comisión de siete de marzo de dos mil catorce señala la transparencia salarial como una de las claves para hacer control sobre la brecha

o sobre la transparencia salarial y en dos mil dieciocho empezamos con una buena noticia

parece que es el primer país del mundo que prohíbe por ley la desigualdad salarial entre sexos y de cualquier colectivo sin importar

el grupo étnico la identidad sexual la nacionalidad o la religión no sabemos todavía el impacto de estas medidas contundentes

que es necesario un plazo de implementación para que podamos evaluarlas habrá que estar muy atentas y lo estaremos pero lo que sí sabemos es que las que estamos llevando hasta ahora

como la propia comisión europea afirma es lento muy lento en euskadi contamos con una estrategia vasca de empleo dos mil veinte y un plan estratégico de empleo dos mil diecisiete dos mil veinte en nuestra opinión es bastante mejorable

continuar incidiendo la reducción progresiva de las desigualdades por razón de género en el ámbito laboral de forma muy muy muy genérica

orientaciones estratégicas no hemos encontrado ni un solo indicador

con esta iniciativa desde elkarrekin podemos pretendemos que se desarrollen contenido y compromisos concretos para las orientaciones estratégicas relacionadas con las desigualdades por motivo de género y en este caso con la brecha salarial y celebramos realmente haber llegado a un acuerdo en este pleno para dar contenido real a la estrategia

responsables plazos recursos asignados que sea liderado bajo nuestro punto de vista por lo menos que participe plenamente el departamento de trabajo y justicia

en su propio departamento el poder detectar este tipo de desigualdades también

parlamento y también la ciudadanía para conocer el impacto de la estrategia y reorientar políticas y recursos a los que se considere necesario

lugar instamos al gobierno a promover junto a los agentes sociales un debate en profundidad para acordar medidas que ayuden a superar la brecha salarial que se extiendan a los planes de igualdad en tercer lugar instamos a realizar informes periódicos sobre la incidencia y características de la brecha salarial en diferentes sectores productivos

el estudio brecha salarial causas de indicadores dos mil doce dichos informes contendrán además recomendaciones con medidas para seguir avanzando en la erradicación

los puntos cuatro y cinco hacen referencia a la sensibilización concienciación prevención

del buzón contra el fraude laboral y las diferentes herramientas de las que se disponen y en el último lugar pero no menos importante ya que está orientado a modificar la normativa para lograr transparencia salarial instamos al gobierno central a agilizar en el congreso de los diputados el debate para aprobar una ley de igualdad retributiva y de transparencia salarial sin mirar a la que se está impulsando desde distintos estados de la unión europea

hoy hemos venido con esta iniciativa de políticas feministas que tal y como ya anunciábamos en diciembre es la primera de una ofensiva social que desde elkarrekin podemos

una ofensiva que pone el acento en cuestiones que interesan que preocupan y mejoran la vida de una inmensa mayoría de vascas y de vascos una ofensiva social que se dirige fundamentalmente a las fuerzas progresistas de esta cámara que somos mayoría

y muy especialmente de la gente que peor lo pasa en euskadi una creciente desigualdad social

problemas en la industria y bolsas de pobreza cronificadas

que ser la base de un trabajo compartido entre las fuerzas progresistas desde elkarrekin podemos vamos a redoblar esfuerzos en esta dirección y a tratar de hacer

sea también mayoría en la agenda de las instituciones vascas eskerrik asko eskerrik asko arana andrea

gracias señora presidenta egun on guztioi bien yo no sé si se me va a

o no porque como aquí parece que solo las fuerzas progresistas van a apoyar esta iniciativa yo no sé

puesto una enmienda que completaba

y además me alegro y celebro el que se llegue a una unanimidad en este asunto porque yo

se puede catalogar de feminista pero yo creo que fundamentalmente en estas cuestiones

es una cuestión de justicia es una cuestión de justicia como ha dicho la proponente y también se señalaba en la iniciativa el empleo es elemento de integración social y como decía la igualdad de oportunidades además de ser un deber de justicia supone un beneficio una herramienta de atracción y de retención del talento que permite acceder a recursos humanos con mayor y diversa formación con mayor experiencia con mayor actitudes más motivado e implicado debido a que se asegura y que se perciben compensaciones que son igualitarias que son en función

de la cultura de valores culturales femeninos o masculinos que tenga la persona la ruptura de ese techo de cristal como aquí se ha dicho supone también además de como digo un elemento de justicia un impulso a la productividad

en todos los puestos de trabajo pero también en los puestos directivos se considera la principal fuente de ampliación para aumentar el talento en los equipos es verdad que la brecha salarial tiene múltiples factores y así la comisión europea

comunitaria ha demostrado su eficacia para eliminar

salariales cuando se recibe por el mismo trabajo retribuciones diferentes pero sí que

comunitaria ha resultado menos eficaz para garantizar el respeto al principio de retribución igual a trabajo de igual valor que es de lo que se trata a pesar de como decía de estos beneficios de la igualdad de oportunidades la desigualdad es un hecho y está ahí y yo creo que es labor de todos los gobiernos de todas las instituciones de todos los agentes sociales

por una parte incrementar el empleo femenino para asegurar esa igualdad de oportunidades y para eliminar esa brecha salarial la mayoría de los países avanzados

pero sin embargo la brecha salarial siguen existiendo y sigue existiendo en todos los países

difícil de combatir es verdad que se van realizando esfuerzos en españa desde el gobierno del partido popular se ha avanzado en

la brecha salarial en dos mil diecisiete se ha recuperado todo el empleo femenino que se había destruido durante la crisis y en diciembre del año pasado más de ocho millónes y medio de mujeres estaban trabajando según los datos publicados por eurostat la brecha salarial se coloca en un mínimo histórico en el catorce coma nueve desde el dos mil doce se ha reducido en cuatro puntos del dieciocho coma siete al catorce coma nueve y

medio punto por debajo de francia seis puntos por debajo de reino unido y más de siete puntos por debajo de alemania también se está reduciendo la brecha de género en pensiones

de maternidad con incrementos en las cuantías de las pensiones hasta un quince por ciento y ese complemento lo cobran ya

en pensiones en un trece por ciento en estos dos años pero hay que seguir avanzando como se ha dicho aquí en la línea de o como han hecho otros países europeos a través

y promuevan actuaciones proactivas en materia de igualdad salarial una puede ser la ley que se ha citado y que también está recogida en la enmienda que después

y también a través de por ejemplo la modificación del artículo veintiocho del estatuto de los trabajadores para

en ofrecer a los trabajadores y a sus representantes información desagregada en función del género sobre los componentes y la cuantía de la retribución para puestos de trabajo de igual valor o la modificación del artículo cuarenta y seis del mismo estatuto de los trabajadores para que las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores adopten estrategias de igualdad salarial a través

se puede y se debe mejorar en materia de igualdad de empleo femenino y de avanzar en la eliminación de esa brecha salarial con relación a la tasa de actividad femenina esta es once puntos inferior a la masculina un cuarenta y cuatro coma tres por ciento frente al cincuenta y tres coma cinco por ciento aunque hay que decir

parciales corresponden a mujeres frente al cuarenta por ciento de las jornadas completas

fundamental como hemos dicho para la inclusión social y la autonomía económica según refleja la encuesta anual

es un problema que ya era crónico en euskadi el de la brecha salarial pero que se ha agravado con un peor comportamiento durante la crisis sobre todo por los sectores

por mujeres de todos los ámbitos según un informe de emakunde el conjunto de las mujeres entre dieciocho y sesenta y cuatro años residentes en el país vasco expresan con absoluta

un enclave en el que se mantienen las diferencias de género y casi ocho de cada diez el setenta y ocho coma seis por ciento consideran que las mujeres no tienen las mismas condiciones laborales que los hombres y casi tres de cada cuatro el setenta y cuatro coma dos por ciento consideran que las oportunidades laborales no son las mismas para las mujeres

y como se ha dicho aquí esto viene corroborado con los datos euskadi se sitúa

de la masculina y como se ha dicho aquí la diferencia salarial se cifra

y como ya es conocido las mujeres ocupan el grueso también en nuestra comunidad autónoma de la contratación a tiempo parcial y también están castigadas por más temporalidad concretamente en la comunidad autónoma del país vasco el ochenta por ciento del trabajo parcial es desarrollado por mujeres y

laboral para equilibrar esas necesidades entre trabajo y familia lo que contribuye a esa segregación laboral

sigue recayendo en un alto porcentaje y es así en las mujeres que les impide en muchos casos promocionar

laboral así como ocupación de ese trabajo informal lo que trae consigo evidentemente ese incremento

a estas cifras y datos hay que unir la segregación ocupacional como uno de los factores que también están en el origen de esta discriminación tal y como señala también emakunde

tipos de trabajo que les impide ocupar posiciones de liderazgo y así existen todavía hoy empleos que se consideran que son femeninos

se remuneran peor existen además numerosos ámbitos de actividad con mayor

de retribuciones suplementarias que lo que hacen no es

esa divergencias salariales en todos los sectores al margen de variables tan decisivas

la duración o el tipo de ocupación en los que la discriminación salarial se materializa de una manera implícita la discriminación también se da de manera explícita en niveles laborales concretos es decir a la misma tipología de contrato duración y ocupación se detectan diferencias

es una cuestión de las que se establece en la

se ha conseguido llegar a un acuerdo que debe de ser estudiado y que debe de ser perseguido por las instituciones en nuestra comunidad también

en los niveles estamos peores y en la ocupación en los consejos de administración en la ocupación en las entidades bancarias en todos esos puestos directivos en los que al final agrava mucho la diferencia salarial entre hombres y mujeres la presencia de las mujeres en algunos casos es

de los indudables beneficios como he dicho de implantar la igualdad de oportunidad que es indudable creo que queda mucho por hacer que se pueden hacer muchas cosas y que la iniciativa que hoy va a salir adelante es un buen camino para continuar

y para acordar entre todos entre los presentes en esta cámara y los agentes sociales y entre otras instituciones nuevas medidas para que realmente dentro

denunciando de nuevo la brecha salarial o por lo menos podamos decir

se nos llena la boca de acuerdos a los que llegamos pero que no van más allá del papel si el foro económico mundial augura que por lo menos necesitaremos

para poder llegar a la igualdad salarial deberíamos de estar muy preocupadas y ocupadas

en intentar que estos plazos se vayan acortando porque últimamente no paran de alargarse las previsiones estamos ante el mayor robo de la historia y no lo digo yo lo dice la onu nos están robando a las mujeres nos quieren empobrecidas

beste herrialde batean okerrago daude el problema este robo

sí gracias presidenta hoy debatimos en este punto del día la iniciativa de elkarrekin podemos sobre

y vamos a debatir sobre la brecha salarial y los socialistas tenemos claro que es imprescindible una actitud proactiva para atajar de raíz la profunda brecha de desigualdad no solo salarial sino social que sigue padeciendo la mitad de la población lo tenemos tan claro que si no fuera por leyes como la de igualdad la que permitió el divorcio sin necesidad de culpar a nadie sino de simple voluntad o la de

hoy las mujeres serian aún menos libres pero somos conscientes de que a pesar de que desde

no hemos acabado con las cuestiones de raíz la dependencia económica que todavía

que hace falta intervención y liderazgo institucional y hace falta corresponsabilidad

a través de la negociación colectiva los socialistas apostamos por eliminar la brecha salarial y el déficit en el empleo de las mujeres y la precariedad de sus vidas

la necesidad de elaborar y aprobar una ley de igualdad salarial y de uso de tiempos con el fin de eliminar esta brechas salarial

y mujeres y que se eleva hasta el treinta y ocho por ciento en las pensiones y consideramos que

es un principio fundamental cuando hablamos de igualdad y de brecha salarial estamos hablando de derechos humanos y consideramos que es fundamental incluir

transversal porque está demostrado que los países más igualitarios y con los índices más elevados de participación equilibrado por sexos en las tomas de decisiones también son los más desarrollados y los que obtienen

económicos los socialistas vascos creemos que deben tomarse medidas para eliminar esta brecha salarial y por eso estamos satisfechos con todo el esfuerzo

a la mejor enmienda transaccional donde se puedan recoger puntos que sirvan verdaderamente para luchar contra la misma desde el ámbito sindical y hasta ahora se han hecho movilizaciones manifestaciones concentraciones coincidiendo con el ocho de marzo este año

más visibilidad a todos estos problemas a todas las discriminaciones que están sufriendo mujeres

salarial y el partido socialista se ha sumado a esta convocatoria

de la constitución señala que todos los españoles somos iguales ante la ley

sigue siendo todavía diferente la brecha salarial se produce en muchos ámbitos diferentes pero también se realiza de una forma sutil

sigue reflejando la brecha salarial el salario medio de las mujeres representa el setenta y cinco por ciento del salario medio contra esta brecha salarial se ha de luchar también en la negociación colectiva pero solo tenemos el treinta y cinco por ciento de la población asalariada

con vigencia y el cuarenta y dos coma nueve por ciento lo tiene prorrogado y un diecinueve coma seis por ciento lo tiene decaído derivado de la falta de acuerdo en la negociación

se da en desempeñar a los hombres más cargos de responsabilidad que las mujeres se da

se da cuando se ocupan mujeres en menos puestos en alta dirección y el desempleo femenino es un tres coma cinco por ciento más alto que el de los hombres y la tasa de paro en nuestra comunidad autónoma vasca es del

y un diez coma sesenta y uno por ciento en los hombres además

de los empleos a tiempo parcial durante la crisis también ha caído el número de horas extraordinarias abonadas

pero sí se han incrementado el número de horas

ha cambiado afortunadamente un poco a partir del dos mil diecisiete pero sin embargo

del abono siguen también siendo mucho más perjudicadas las mujeres de esas horas que se pagan siguen cobrando también mucho más

tanto las mujeres que siguen realizando un mayor número de horas extraordinarias sin ser abonadas con lo cual también ahí

en la diferencia que se produce en la realidad entre

y las mujeres incluso también en el abono

horas extraordinarias siguen siendo las más perjudicadas todo esto en suma ahonda en la brecha salarial

y el principal problema en muchas ocasiones es la posibilidad por parte de las mujeres de poder probar precisamente la existencia

realmente ha dificultado que puedan judicializar y reclamar esa igualdad en muchísimas ocasiones porque esa

muchas veces en acuerdos individuales entre la empresa y algún trabajador que

por parte de la compañera porque no existe ninguna publicación ninguna transparencia de lo que realmente están cobrando otros compañeros de las empresas y eso como he dicho dificulta luego

y exigir que se corrija esa brecha salarial por eso en la lucha contra la brecha salarial es muy importante que se aprueben

de publicar los salarios abonados tanto en salarios

en otros países de la unión europea como alemania o irlanda la brecha salarial debe eliminarse a través de esta vía y también a través fundamentalmente de la negociación colectiva evidentemente le corresponde también al gobierno de españa

del gobierno dar pasos para la eliminación de esa brecha salarial como puede ser por ejemplo el agilizar

la aprobación de esa ley de igualdad retributiva y transparencia salarial que en la propia enmienda transaccional

nosotros ponemos en valor la importancia que tiene porque

este es el camino fundamental para que esa transparencia pueda servir para luchar luego jurisdiccionalmente o dentro de las propias empresas

vital es una herramienta fundamental es una herramienta que se ha visto que ha sido muy efectiva en los países que se ha puesto

que se agilizara precisamente la aprobación de esa ley luego dentro de nuestra enmienda transaccional también recogemos puntos importantes como la elaboración de un plan

servir para reforzar políticas que se lleven a cabo desde el departamento de trabajo y empleo u otros departamentos del

tocan temas referentes a la brecha salarial o la igualdad entre

foros competentes este debate en profundidad en los foros competentes que para nosotros en nuestra enmienda a la totalidad consideramos que podía ser la mesa del diálogo social y luego impulsar

periódicos sobre incidencia y características de esa brecha salarial y luego también hace referencia

a la incorporación de herramientas al buzón antifraude existente en la actualidad dentro del departamento de trabajo y justicia

en la denuncia de casos de la brecha salarial este buzón ya está puesto en marcha desde el año dos mil once recibe esas quejas y esas denuncias

es una herramienta más porque existen otras herramientas para presentar las denuncias en materia de brecha

como son las inspecciones de trabajo territoriales donde bien se realizan vía ventanilla o se realizan también a través del correo electrónico la recepción en esas inspecciones territoriales de todas las denuncias que se presentan también en el ámbito de la brecha salarial y que no podemos olvidar que son herramientas que están ahí y que
el buzón lógicamente completa esa herramienta y luego también la necesidad de realizar amaitzen joan sánchez andrea sí ya termino presidenta gracias de promover esas campañas de

campañas desde luego que se vienen realizando también aunque se puedan reforzar desde la inspección de trabajo para luchar contra esa brecha salarial y luego

dentro del congreso de los diputados el debate para aprobar la ley de igualdad retributiva y transparencia salarial es algo fundamental y es lo que sí ha demostrado que es realmente

del acuerdo y de la enmienda transaccional que mejora la proposición original porque yo creo que encaja mucho más todos los puntos dentro de todos los que tienen

hijos también lo comentaba la señora etxebarrieta y ha aportado los datos al respecto

pese a la incorporación de la mujer al mercado laboral durante las últimas décadas

la mujer dedica menos horas a su empleo según los últimos datos de la organización internacional del trabajo

forman parte de la población activa mientras que el porcentaje es del cuarenta y nueve coma seis por ciento en el caso de las mujeres de cara al futuro

al ritmo actual se necesitarán más de setenta años para acabar con la brecha salarial

nuevas medidas específicas para atacar este problema euskadin soldata arrakala gaur egun gizon eta emakumeon artean

se trata de cifras contundentes que ponen de manifiesto un problema cuyos factores son como explicaba en euskera en muchos casos

esta dificultad provoca que la conciencia social no sea paralela a la magnitud y la importancia de este problema y debemos visibilizar esta situación y socializar el problema

solo si somos conscientes podremos poner medios para erradicarlo

que se benefician de retribuciones suplementarias que amplían las divergencias salariales entre los sectores fuera de los tipos

pero al margen de variables tan decisivas en el tema de la brecha salarial como la tipología del contrato la duración o el tipo de ocupación

implícita la discriminación se produce también de manera explícita en niveles laborales concretos es decir a misma tipología de contrato duración y ocupación se detectan diferencias entre los salarios percibidos por mujeres y hombres

por lo tanto la brecha salarial responde a causas variadas y complejas y su eliminación requiere del mismo modo de un enfoque a distintos niveles actuando entre otras cuestiones

y los estereotipos de género y la cultura empresarial que se genera a partir de creencias y factores de discriminación como pueden ver una vez más estamos hablando de desigualdad

y para poder hacerles frente es necesario el compromiso

apelo a ese compromiso y que trabajemos conjuntamente legebiltzarkideon ardura da administrazioaren ardura da enpresa komunitatearen ardura da

ditugu islandia eta alemania adibidez islandia y alemania acaban de adoptar medidas legislativas novedosas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad salarial entre otros casos en islandia por ejemplo todas las empresas de más de veinticinco trabajadores o trabajadoras

por otro lado el sistema de indicadores deberá ser testado con empresas y ajustado a la metodología para elaboración y diagnóstico de planes de igualdad

facilitando información y poniendo en marcha iniciativas que ayuden a disminuir la brecha y aprovecho la oportunidad para recordarles que todavía queda

de transacción se complementan de un modo muy apropiado a fin de concretar medidas necesarias para seguir avanzando en la erradicación de la brecha salarial que puede ser una utopía como comentaba la señora etxebarrieta pero si me gustaría hacer esta reflexión de

las instituciones las normas y las relaciones individuales están organizadas en un principio más perfecto que la sociedad de tomas moro vivimos en una sociedad que es

ya hemos avanzado y seguimos avanzando nos estamos acercando a esa utopía eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga anderea

buenos días gracias presidenta señoras y señores parlamentarios consejeras consejeros buenos días de nuevo bueno presentamos esta iniciativa entendiendo que desde su trasferencia a la comunidad autónoma vasca se hace necesario

que por ley también les corresponde los archivos provinciales conservan siglos de documentación de patrimonio documental de álava

dispuestos a ser trasferidos además la ley

de relaciones entre las instituciones comunes de la comunidad autónoma vasca y los órganos forales de sus territorios históricos la ley de territorios históricos

forales de los territorios históricos tienen competencia exclusiva que ejercitaran de acuerdo con el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos en la siguientes materias y ahí se nos comenta qué materias en el punto número doce archivos bibliotecas museos

instituciones serán de titularidad en ese tema de la gestión o de la competencia del territorio histórico hemos planteado esta iniciativa y también hemos realizado alguna otra una pregunta

y vemos que desde luego quedan cosas por hacer queda un camino por recorrer y por ello también esta iniciativa también en otras instituciones como las juntas generales se han planteado iniciativas conectadas y concretas

bien para centrar esta proposición no de ley miremos los antecedentes el archivo histórico provincial de álava me voy a centrar un poco en ese ejemplo

y se instala en unos locales del instituto de segunda enseñanza

aquí mismo en estas salas en algunas de estas dependencias o de este

estuvo allá en mil novecientos cuarenta y seis el archivo provincial

en mil novecientos setenta y seis se traslada a la casa de la cultura

y en dos mil cuatro se traslada a la actual sede del paseo

el edificio y sede actual del archivo se construyó entre dos mil uno y dos mil dos y desde el uno de junio de dos mil cuatro se abrió al público el edificio el archivo provincial el de álava no cada realidad es distinta en los territorios históricos pero este hoy me viene porque también se ha tratado en otras instituciones como las juntas de álava cuenta con veintidós kilómetros lineales de estanterías es una capacidad considerable por comparación

del total de capacidad el archivo ocupa ocho kilómetros aproximadamente el funcionamiento del archivo provincial es doble por un lado como archivo intermedio de la administración central

la administración periférica en la provincia con todas las delegaciones subdelegaciones fogasa inspección de trabajo dirección provincial de tráfico centro penitenciario etcétera y como archivo histórico su función es la de recoger los protocolos notariales del territorio con más de cien años de antigüedad y la conservación permanente de los archivos

conserva veintinueve fondos y cuatro colecciones documentales y el fondo documental más importante voluminoso y consultado del archivo es el de los

volúmenes en su depósito junto con la documentación notarial también son importantes los fondos judiciales de

así como algunos fondos privados pequeños pero de gran interés histórico y documental el archivo realiza también labores de investigación labores de difusión de divulgación realiza exposiciones conferencias jornadas cursos y además

continuamente visitas guiadas de escolares estudiantes estudiosos

bien la titularidad de los archivos histórico provinciales corresponde al estado pero mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil once mediante una comisión mixta de transferencias se traspasó a la comunidad autónoma del país vasco por real decreto tres mil sesenta y nueve barra mil novecientos ochenta en materia de gestión de los archivos de titularidad estatal

en su virtud se transfirió a la comunidad autónoma del país vasco la gestión de los archivos de titularidad estatal comprometiéndose la comunidad autónoma a ejercer dentro de su ámbito de gestión

suscritos entre ambas administraciones el estado se reservaba las funciones como titular de los inmuebles y de las agrupaciones documentales

y sobre los que se encuentran en depósito procedentes de los servicios o centros de titularidad estatal pues bien en el acta de la comisión mixta de transferencias a la que antes he hecho referencia de veintidós de junio de dos mil once ya se preveía que la administración general del estado asumía la declaración verificada entonces por la representación

su acuerdo en el sentido de que se procurara que las funciones transferidas en materia de la gestión de archivos de titularidad estatal

por los órganos forales de los territorios históricos del país vasco por lo que las relaciones de colaboración interadministrativa la suscripción de los convenios correspondientes y cuantas

términos de acuerdo y traspaso acordado se procurara que se articule con los territorios históricos del país vasco a quienes se confiará el ejercicio de las funciones transferidas es decir ya había una advertencia en el sentido de procurar que esa transferencia recibida por la comunidad autónoma después se delegaría en los diferentes territorios históricos y posteriormente

se suscribió el convenio entre el ministerio de educación cultura y deporte y la comunidad autónoma del país vasco sobre gestión de los archivos de titularidad estatal

iniciativas mociones en las juntas generales de álava sobre la puesta en marcha de los procedimientos legales para la materialización de la competencia garantizando

de la cuestión la financiación correspondiente y suficiente las actuaciones que se llevaron a cabo como consecuencia de estas

se realizaron y en concreto se llevaron a cabo gestiones con el fin de que la comisión mixta de transferencias gobierno vasco y territorio histórico de álava adoptara el correspondiente acuerdo de transferencia fue rechazado en su momento el planteamiento realizado desde la comunidad autónoma es decir desde el gobierno vasco por el entonces diputado general la propuesta de acuerdo planteada por qué precisamente al no ir acompañada de la suficiente financiación acorde con las funciones y servicios a transferir y eso se ha ido poniendo de manifiesto en algunas ocasiones no obstante el interés en asumir por parte de la diputación foral de álava dicha transferencia con un efecto

que tendría que ser normal y lógico en relación con la asunción de una transferencia de esas características por esa gestión concreta

bien también ha habido otro tipo de iniciativas

en las juntas generales de álava en relación con ese tipo de cuestiones y lo que hay que dilucidar desde luego es la financiación

de esa transferencia y para que sea lógico y normal nosotros hemos presentado esta iniciativa parlamentaria en relación con seguir

este tema en juntas generales de álava con la aprobación de la moción de parte de una moción que se presentó en las juntas generales de álava que instaban a las diputación foral de álava en su caso a que recabe del gobierno vasco la transferencia de la gestión del archivo

nuestro pues bien está claro que por ahí van las cosas

acabe de recorrer y por eso a la vista de ese acuerdo foral nosotros hemos solicitado ante el pleno del parlamento vasco la aprobación de la siguiente proposición no de ley

sigue siendo la definitiva materialización con la correspondiente financiación de esa transferencia

que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a que realice los trámites oportunos para completar la transferencia de la gestión de los archivos históricos provinciales a los respectivos territorios históricos y por otro lado

a promover esa transferencia y ese acuerdo con un acuerdo de financiación suficiente a los archivos históricos provinciales acorde con las funciones y servicios a transferir de tal forma

en los costos a soportar por los presupuestos de los territorios históricos nosotros pensamos que esto es lógico que es normal a la hora de establecer esa transferencia con los órganos forales de los territorios históricos llamados

estamos hablando de muchas cosas estamos hablando de patrimonio estamos hablando de patrimonio histórico estamos hablando de patrimonio documental estamos hablando de nuestra historia estamos hablando de garantizar en los territorios históricos

todo lo que sea de producción política pública notarial judicial dentro de nuestro territorio histórico de nuestros tres territorios históricos

eficaz eficiente modernizadora de la administración y sin duplicidades muchas gracias

presidenta yo también podía haber traído el caso que más conozco que es el de

en unas condiciones como conoce el señor barrio totalmente diferentes dado que en el dos mil catorce

se produjo el acuerdo de transferencia entonces no voy a reiterar cuál es el caso guipuzcoano pero sí me voy a posicionar en común respecto a la postura mantenida a través de la enmienda de totalidad presentada

el señor barrio y todos todas sabemos que aquí la cuestión no ha sido

en ese sentido puesto que había polémica entre las fuerzas políticas sobre quién finalmente debería de quedarse con esa

de la competencia transferida de gestión de los archivos provinciales yo he leído varios de los debates que se han sucedido en este parlamento y que pese a que se argumentó mucho jurídicamente la cuestión no era tanto jurídica porque ambas posturas mantenían un apoyo

política entendiendo que unos querían un sistema nacional de archivos

común de archivos un servicio vasco de archivos que estuviera integrado gestionado directamente por parte de los órganos comunes frente a los que mantenían efectivamente que la titularidad

archivos y por tanto la ejecución de la gestión de los archivos provinciales debería de recaer en los órganos forales

ha pasado mucho tiempo y el tiempo no ha pasado en balde finalmente yo creo que las fuerzas políticas vascas presentes vamos a poner por encima

de modelo de país y que se están debatiendo en otros foros el que se vaya avanzando en una ejecución lo más óptima posible para la ciudadanía de esa trasferencia que efectivamente tenemos en nuestras manos de ahí la

de totalidad presentada nosotros también pensamos que es perfectamente compatible la enmienda de totalidad presentada con no solo con esa gestión más óptima de la competencia

que hacen los y la ejecución de los órganos forales directamente que han venido haciendo por la proximidad de estos archivos o de archivos muy similares sino

el otro debate lo tendremos próximamente cuando debatamos el anteproyecto de ley de archivos que tendremos ocasión de poner también

mantiene que hay que ir avanzando que se ha dado el debate y que por encima

está el cómo y el cómo es que finalmente haya un acuerdo al menos parcial en la cuestión de que ese alguien haya alguien que se encargue

pedimos las competencias para ejecutarlas y hacerlo de la mejor manera posible obviamente nosotros no renunciamos

con una ley de archivos que establezca una política vasca de archivos

un encaje nacional de todos los archivos incluso debemos de hablar de los privados dentro de esa ley vasca y que se haga además con los criterios que ahora

vienen implementándose en las cuestiones

dentro de la comunidad autónoma del país vasco que son los criterios de gobernanza y gestión compartida en la que la coordinación para una política vasca

concurridas pues al menos se haga de la mejor manera posible efectivamente no voy a contar cuáles son las condicionantes

el señor barrio y cuáles son las diferencias es cierto que en unos territorios los acuerdos han sido más amplios entre las distintas fuerzas políticas

confirmar el señor erkoreka y en otros sitios como

generales de álava hay unas mayores diferencias en cuanto a la titularidad y también en cuanto a la financiación que las ha explicitado y detallado el señor barrio por eso

global sí a un acuerdo para una gestión compartida

interinstitucional del ejercicio de la competencia que hemos conseguido que esté en nuestras manos y hacerlo lo mejor posible teniendo en cuenta aquellos órganos

y por ubicación y porque han venido ejecutándose esas trasferencias por ejemplo en caso de gipuzkoa que se han ocupado de esos archivos históricamente pueden ayudar a hacerlo dentro eso sí como he dicho antes de ese sistema común de archivos que entenderemos que todos estaremos de acuerdo a conformar en la futura ley

archivo pendiente de trasferir es el archivo histórico provincial de álava

más pronto que tarde se terminará trasfiriendo porque existe una sintonía evidente entre

en este momento en manos de los mismos partidos políticos un contexto diferente al cual veíamos en la anterior legislatura

a cada transferencia del archivo y a adecuar esta financiación a las necesidades pero me da la sensación de que se hace con una foto un tanto caduca dado que

histórico provincial de álava se han dado medidas de ahorro muy importantes tanto en la factura eléctrica del edificio que se ha renegociado ha bajado alrededor de un cuarenta por ciento también en la instalación de un circuito cerrado de vigilancia también un ahorro importante y por tanto los costos de mantenimiento de dicha transferencia no son las mismas hoy que hace algunos años esta mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos se verá incrementada aún más en el momento en que se

entre un archivo foral y un archivo histórico provincial que se encuentran actualmente

etcétera por tanto si

en álava en gipuzkoa por ejemplo uno de los archivos el foral está en oñati el otro está en tolosa en bilbao están

si hablamos de sinergias en el caso alavés son muy importantes

que devinieron en un rechazo a dicha transferencia porque los costes de mantenimiento también han cambiado lo que sí sigue siendo la misma o parecida es la dotación que se le tiene que dar a dicha

en la ley dos barra dos mil siete de metodología de distribución de recursos que es la que está actualmente en vigor y que es una ley justa y es una ley equitativa que es la que normativiza cómo se distribuyen los recursos horizontal y verticalmente

y es una ley que se basa en renta recaudación y población de cada territorio histórico por eso lo de equitativa y justa y la distribución que le toca en este caso a álava que es donde focaliza su atención el señor barrio en su pnl es del quince por ciento el treinta y cinco por ciento gipuzkoa y el cincuenta por ciento aproximadamente

que se le presupuesta a esta transferencia en el cupo de los dos coma cinco

van para álava y yo puedo decir que son suficientes en el contexto actual y que van a tener un impacto prácticamente neutro aun el acuerdo no está cerrado pero moviéndonos en el marco

el contexto anterior es decir que incluyendo el balance en el balance foral el archivo foral y el archivo histórico estamos hablando de un

en el territorio es decir que no va a costar ni un solo euro a los ciudadanos

la iniciativa que ha traído el grupo popular vasco a este pleno y que hoy nos toca debatir tiene que ver con transferir la gestión de los archivos históricos provinciales

para los presupuestos de los tres territorios tanto la propuesta presentada por el señor barrio como la enmienda a la totalidad que defienden los grupos que integran el gobierno

o plena titularidad sin embargo para nosotras para elkarrekin podemos hay que poner en el centro del debate y hay que poner en valor

de las profesionales y de los profesionales y las reivindicaciones de las personas que llevan mucho tiempo gestionando estos archivos

euskera y deporte se han producido las comparecencias de los diferentes directores de los archivos históricos provinciales así como de la responsable del servicio de archivo biblioteca

estas intervenciones se han producido en el marco de la elaboración tanto de la ley de patrimonio cultural en la que nos hayamos inmersos

que parece que el gobierno vasco la va a dejar para el año dos mil diecinueve después de varios intentos en otras legislaturas para empezar

de las profesionales del sector tenemos que tener claro la función de los archivos actualmente que nos se limita

que son consultados por eruditos no solo se limitan a la conservación del patrimonio documental sino que su propósito principal es la difusión de la información de ese patrimonio

los garantes de la transparencia y del buen gobierno más importante que de quién es la competencia es el que estén bien gestionados y garanticen el acceso a la información y a la cultura lo que realmente necesitan los archivos del país vasco es una ley de gestión documental integral en la que se incluya las políticas de transparencia y el acceso a los documentos tanto de papel como electrónicos

de documentación sin valor histórico y la conservación permanente de los documentos que sí tengan ese valor no existe un sistema nacional de archivos de euskadi

patrimonial de toda la administración pública vasca local foral y autonómica e incluso

que conserven patrimonio documental con valor histórico como pueden ser la iglesia los sindicatos porque hasta las colecciones de titularidad privada si se incluyen en el patrimonio documental tendrían carácter público

traspasos de competencias deberíamos instar al gobierno vasco a hacer una ley consensuada con los ámbitos institucionales implicados y que desde el principio de su redacción cuenten con las asociaciones profesionales y los técnicos para que se pueda construir un sistema que sirva realmente para el desarrollo de las políticas públicas comunes en euskadi y para mejorar

la administración pública vasca hay que recordar que los archivos históricos provinciales de los que hoy estamos hablando fueron creados en mil novecientos treinta y uno por la

la documentación notarial con más de cien años y la generada por la administración general del estado en cada provincia en julio de dos mil once se transfirió a la comunidad autónoma vasca la gestión y el mantenimiento del servicio de los tres centros y la administración central

del edificio y la documentación que conserva igual que en el resto de las comunidades autónomas curiosamente el resto de los archivos provinciales se transfirieron en los años ochenta a sus respectivas comunidades autónomas así que aquí en euskadi no debía interesar mucho esa transferencia para esperar hasta el dos mil once desde entonces

ninguna visibilidad de facto el gobierno vasco no gestiona realmente los archivos les da una subvención anual como ya he comentado al principio una de las funciones principales de un archivo es facilitar el acceso y la difusión de su documentación

es esencial para el acceso electrónico a las imágenes y descripciones de los documentos hasta el dos mil once esto se hacía dentro del portal de archivos

desde entonces no tiene ningún sistema de gestión de la documentación es inconcebible

y descripción de los documentos al que no tenemos acceso electrónico porque el gobierno vasco

y que tenga la documentación de los protocolos notariales en un limbo mientras deciden y no deciden transferir las competencias de las diputaciones forales no se hace nada en ese aspecto porque lo que tiene que ver con el trabajo diario presta los siguientes servicios

y localización de los documentos en los fondos documentales que deseen consulta presencial de documentos consulta directa de documentos originales

uso de la biblioteca auxiliar del archivo actividades culturales y educativas visitas pedagógicas cursos y conferencias

exposiciones formación de becarios en prácticas prestamos de documentos para exposiciones prestamos de documentos para la administración y un largo etcétera les invito

no los hayan visitado a que comprueben que hay en estos archivos instalaciones perfectamente equipadas a las que no se les da uso y que adolecen de falta de trabajadoras y de personal

que permanecen vacíos sin restauradores y sin trabajo tenemos que dar una solución a esta realidad y digo tenemos porque a pesar de que la titularidad de los edificios

la administración autonómica puede ampliar las funciones de los archivos históricos provinciales encomendándole funciones de archivo intermedio histórico de los respectivos sistemas autonómicos

los cubre el gobierno vasco y queremos proponer algo constructivo y en lo que los propios profesionales estarían de acuerdo

y de gestión documental integral por qué no proponemos que se hagan convenios de cooperación interinstitucionales que exista un ámbito archiveras y archiveros vascos se reúnan para consensuar políticas procedimientos usos compartir espacios existe un consejo de archivos que no funciona ni se reúne y existe la asociación de archiveros bibliotecarios y documentalistas de euskadi que es un ámbito no oficial hay además

que quién tiene la competencia del archivo y es la destrucción de los mismos

un artículo firmado por veinticinco historiadores titulado

denunciando que la junta de expurgo de expedientes judiciales de euskadi creada en dos mil cuatro había destruido más de setenta toneladas de documentación de los ámbitos civil penal social y contencioso administrativo en esta junta hay tres juristas y un representante del departamento de cultura del gobierno vasco director del archivo histórico de euskadi

con su destrucción se limitará la posibilidad de hacer historia de forma rigurosa

del derecho a la verdad ahí es donde deben intervenir las instituciones para impedir estas tropelías de eliminación de fuentes judiciales

dos mil cartas históricas robadas de archivos públicos y privados de entre mil seiscientos cuatro y mil ochocientos noventa y cinco de euskadi navarra extremadura y cataluña

de archivos vascos en paradero desconocido ese es un verdadero problema porque me temo que no estén digitalizadas y que sea un patrimonio perdido para siempre su propiedad

su reproducción o digitalización sí lo hubiera hecho

que nos ha presentado el pp y a la enmienda de totalidad vamos a votar en contra porque creemos que los archivos de bizkaia gipuzkoa y áraba deben estar gestionados por el gobierno vasco y formar parte de un entramado o sistema de archivos de euskadi

de euskadi gestionado por el departamento de cultura y los archivos administrativos que gestiona el departamento de hacienda y administración pública es necesaria la coordinación

hacer las leyes que tocan de gestión documental integral en mor de ofrecer a las ciudadanas el acceso a la documentación

consultar a las y los profesionales antes de hacer un baile de competencias que no aportan nada al funcionamiento y a la modernización del patrimonio documental

es que todas tengamos acceso a los archivos y a los documentos históricos ya que sin archivos no hay memoria y un país sin memoria como ustedes ya saben no sabe ni de dónde viene

traspasoa dela bakarrik en materia de gestión

bada guztiz beharrezkoa fundamentala eta zergatik pues porque nuestra memoria está ahí está atesorada ahí y la memoria pensamos que se pierde o se puede olvidar si no se investiga que es imprescindible consultarla y que esta

puedan tener más fácil su trabajo pero sí pensamos que lo único sensato y razonable en relación con esta cuestión es

estén en una sola mano y que sean competencia del gobierno vasco pero que sean competencia real no gestión

baina hori da benetan arazoa daukaguna eta zein da arazoa que en el estado de las autonomías a través de esta ley madrid dispone

no queremos por qué porque al estado se reserva la titularidad y

se la pasa a las personas cuando van haciendo estos acuerdos y se las encomienda en esos términos es decir se viene a decir desde madrid ustedes no pueden tomar tampoco aquí decisiones de calado en este caso sobre los archivos pero cargan con todo el mochuelo de la gestión y del pago de las cosas en esos acuerdos que hemos hecho por eso planteamos una cosa muy clara

y las competencias plenas en todos los archivos y la gestión a través del gobierno vasco eta ikusten dugu gainera hori posiblea dela

si considera que esos archivos son de interés porque se refieren a la historia de los territorios históricos o por alguna razón de ese tipo con lo cual nahiz eta

gauza bat eta horregatik planteatzen dugu planteatzen duguna la gestión sin titularidad del bien sin capacidad de decisión no tiene absolutamente ningún sentido

estamos en un parlamento estamos en una institución tiene que exigir pedir cosas y hacer control y animar a que alguien haga algo pues no deja de ser una declaración de intenciones pero no tiene mucho

no de ley en relación con una propuesta que se hace por otro grupo parlamentario no queremos animar queremos que se haga efectivo lo que queremos es hacer a lo que tenemos derecho y gestionar horregatik ez dugu ikusten ere bestearen

sí han quedado claras podemos y bildu

pues el neocentralismo vasco ese es el modelo que defienden un nuevo centralismo vasco y nosotros

foralistas nosotros pensamos que va haber siempre

así que nosotros en la dicotomía de dónde se instalan los archivos provinciales

porque hablan de cuestiones que tienen que ver con nuestro territorio histórico con su realidad conectan la historia foral con la historia provincial en términos políticos o en términos institucionales así que es lo ideal más que en un gran archivo que ya va a tener otras funciones

que nosotros vamos a defender también miren no hay que poner tan de manifiesto y

en este tema es un mero registro público lo importante de todas maneras en este tema que de algo vivo como son los archivos es su funcionamiento

y de conocer nuestra historia y de tenerla como elemento vivo y poder seguir investigada analizada ese es el elemento fundamental no tanto una titularidad que es una inscripción registral

ampliar en personal en capacidades en gestión o sea que en ese sentido yo creo que es irrelevante ese tema y lo importante es lo otro dónde se ubica cómo se ubica y en relación con ese

que representa esa gestión efectiva de archivos provinciales

eso se complete para que cuando llegue el proyecto de ley de patrimonio documental de archivos

avance con esta racionalización que hoy se piden en relación con los archivos

pues para precisamente para que ese proyecto de ley no vea no se vea limitado por una

esa racionalización desde luego que el archivo de euskadi con los archivos forales en este caso con más junto con los provinciales es absolutamente compatible

hablado de pues bueno que el camino que se va a recorrer ha hablado de una serie de ahorros que van a garantizar

que ese efecto neutro de la trasferencia se puede lograr bueno pues esperemos que eso sea así antes no existía esa claridad en relación con el efecto neutro sobre todo en lo que tiene que ver con el archivo provincial de álava y por eso mismo señor arruabarrena decía qué se pide pues bueno que se analice efectivamente

el costo del archivo provincial de álava y que ese efecto sea neutro puntualmente

no repercuta negativamente en la gestión de la diputación foral de álava y de los órganos forales en relación con este tema la señora garcía ha hablado de los profesionales nosotros presentamos esta iniciativa aquí

archivísticos nos lo han pedido nosotros hemos consultado nosotros no se nos ha ocurrido a nosotros de buenas a primeras efectivamente entendíamos políticamente que la trasferencia de los archivos provinciales a los órganos forales de archivos pues era lo normal y lo correcto pero políticamente pero también es que nos lo han pedido

de esos archivos de ese patrimonio documental a través de esta fórmula o sea que por eso nosotros también hemos venido perfectamente asesorados por los

que los archivos son algo vivo decía que no han tenido visibilidad nosotros pensamos que sí nosotros pensamos que sí han tenido visibilidad son algo vivo no solo son un gran almacén

y lo conocemos y valoramos desde luego el trabajo

centro cultural se puede decir los archivos yo conozco esencialmente el archivo provincial de álava y son un centro cultural de difusión de divulgación de investigación se dan conferencias se dan jornadas se dan cursos la gente lo visita

yo creo que conectada además a una realidad cultural universitaria yo creo

que son algo vivo y que desde luego y nosotros desde luego para finalizar y lo hemos visto y en esta legislatura se interpeló en juntas generales a la diputada de euskera cultura y deporte la señora martínez luna en un pleno de control que tuvo lugar el uno de junio de dos mil dieciséis acerca

en relación con la transparencia y si iba a defender la diputada la financiación suficiente acorde la diputada contestó admitiendo que los fondos de archivo constituyen un gran patrimonio para nuestro territorio histórico y por ello lo más adecuado es que sean gestionados por las propias instituciones forales de cada territorio

y añadió también que la diputación foral y el gobierno vasco estaban dialogando para concretar las funciones y servicios a transferir comprometiéndose a defender la financiación suficiente y que

cumpliendo así las mociones antes mencionadas eso que

y además decía que en eso iba a trabajar eso es lo que nosotros pedimos en nuestra proposición no de ley
bien amaitu mesedez barrio jauna sí acabo señora presidenta votaremos a favor de nuestra

nos abstendremos en relación con la iniciativa que presente el gobierno queremos que se siga animar desde luego no es la palabra efectivamente señor arruabarrena

esto esté resuelto ya y a satisfacción de todas las partes muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

gracias señora presidenta me he debido de explicar fatal señora garcía

de explicar fatal porque yo en ningún momento he hablado de que lo importante era quién lo ejercía quién lo ejecutaba y de quién era la competencia a quién se había transferido

de la accesibilidad de todos esos archivos y de una gestión compartida e integrada

que permita y lo he dicho además según el partido socialista su posicionamiento un sistema nacional de archivos con una política vasca de archivos que eso sí parta de una gestión coordinada e integral de las diferentes instituciones

en ningún momento hemos renunciado ni a nuestro posicionamiento ni a cómo se puede debatir eso en la futura ley de hecho

forma parte de un proyecto que presentamos en su día cuando gobernaba el lehendakari lópez por lo tanto me suena muchísimo lo que pasa es que la cuestión era muy concreta y muy determinada y yo sí he dicho

llega ese consenso en torno a la ley de archivos mientras llega hay que avanzar y se puede avanzar porque de hecho

dos mil catorce ya se avanzó y era el señor garitano y conseguimos

común quiero decir que lo mayor no deje de gestionar lo importante

estén a disposición de la manera más optima de la ciudadanía ya nos encontraremos a mí me consta que el gobierno vasco está hablando con las diputaciones forales de cara

afrontar esa ley de archivos y como diseñarla con participación de la sociedad vasca me consta yo no sé cuándo esos avances podrán verse mediante la presentación del proyecto pero espero y comparto con usted que vayan

en esa línea con respecto a que podía haberse dicho algo más que se podía haber creado mientras debatimos la ley de archivos

entiéndalo con cariño con una enmienda lo podíamos haber arreglado porque la propuesta

no me parece que sea a desdeñar mientras

consenso sobre el acuerdo legislativo marco se puede establecer un consejo que permita una mayor participación lo digo

la señora goirizelaia también comparto que tiene que haber un sistema nacional de archivos una política común de archivos

con respecto a que esto es una cuestión de la titularidad del estado y

tiene otro modelo el tema es pactar un modelo en el que nos sintamos representados todas las fuerzas políticas y las tradiciones políticas de este país por eso yo no diré

pero sí entiendo que dentro de un objetivo común en esta iniciativa en concreto y en la futura ley de archivos habrá que hacer lo máximo posible para que

y la que no lo es como es la mía podamos caber y sea de una manera lo más óptima posible y más plural porque solo aquellas que se hacen desde esa manera y con una gestión compartida de las competencias que tengan en cuenta a todos los agentes institucionales y sociales

de la propia norma muchas gracias eskerrik asko romero anderea

yo en mi intervención inicial he explicado el motivo por el cual la transferencia ha tardado en venir a euskadi y es que reclamamos no solo la transferencia de la ez bakarrik kudeaketa eskumena bera

porque existe un marco legal que lo avala es posible hacerlo y

la gestión ahora no significa el abandono de ninguna estrategia política sino un paso positivo mientras labramos el encuadro global de nuestro encaje en el estado con la

legislatura en todo caso propongo a esta cámara el enfocar los esfuerzos en la nueva ley de archivos que el gobierno aprobará

el encuadre de los archivos en euskadi en cuanto a la localización forales o no

históricamente los archivos históricos provinciales se han situado cerca de los

cerca de ellos en todo caso no voy a el debate a la futura ley de archivos en la cual cada uno

cuál es nuestro modelo teniendo en cuenta que los límites del marco legal

bai eskerrik asko lehendakari andrea señor barrio siempre me hace volver aquí como me contesta

pues con sus dotes habituales me hace volver aquí para tenerle que contestar cuando no tenía ninguna intención mire que me hable usted

cuando lo que estamos planteando es poder tener lo nuestro

decidir sobre ello y hacer lo que nos parezca oportuno en relación con eso desde el partido popular no le voy a poner calificativo pero igual usted tiene un problema no ya de madurez sino de dislexia de que está en un sitio y en otro de que no sabe muy bien donde tiene la mano derecha bueno esa sí sabe muy bien donde la tiene donde no sabe es donde tiene la izquierda es decir un problema que yo desde aquí no le puedo arreglar

es muy importante y le voy a decir por qué es muy importante la titularidad porque le voy a poner un ejemplo que se entiende perfectamente y que tiene que ver con los papeles de salamanca los famosos papeles de salamanca que han estado dando vuelvas por ahí por el mundo que se acordó que se

que se recurrió que el tribunal superior de la comunidad de madrid dijo que no

ha llegado algo de eso en el año dos mil trece

y sabe dónde están en manos del partido nacionalista vasco

entonces por eso es importante la titularidad de las cosas para poder hacer bien el trabajo que nos encomiendan y lo que nosotros planteamos ez dauka inongo arazorik ez langileekin

egun on guztioi venimos a tratar en este último punto del orden del día la gestión de los instrumentos financieros

y la modernización de las empresas fomenta el emprendimiento y promueve la innovación

cuál es el problema que tenemos a día de hoy con estos fondos por un lado la falta de transparencia y por otro lado una gestión cuanto menos cuestionable

el gobierno anuncia la creación de un fondo de doscientos cincuenta millónes de euros para garantizar el arraigo de las empresas en euskadi un fondo público privado un año después

utilizando un capital cien por ciento público y comprando a una empresa como es kutxabank con lo cual era un capital

akzioak kutxabanki eta ez merkeagoak burtsan no hay respuestas a estas preguntas a día de hoy

la desinformación la arbitrariedad y una gestión cuanto menos deficiente de estos fondos y detrás de estas respuestas está

que en realidad se ha convertido en una ventanilla oscura para las empresas donde no se sabe lo qué pasa y lo que es peor donde no interesa que se sepa tampoco

y explicaré todas estas respuestas la opacidad la spri encarga la gestión de estos fondos a una sociedad

de gestión de capital riesgo del país vasco nuestro grupo hizo varias preguntas para sabe cómo esta sociedad gestiona estos fondos preguntamos

hay procedimientos de designación de los representantes del gobierno vasco en las empresas participadas no los hay hay protocolos internos para trasladar esta información desde los representantes en las empresas hasta el gobierno vasco no los hay

el secretismo preguntamos también al gobierno por treinta y seis empresas en crisis

expresamente que dado que se trata de empresas privadas la información que compartimos con estas no es de carácter público excepto que desemboquen en la aplicación de algún instrumento de apoyo público

y entonces se nos dijo que la información en cuanto a la relación de estas empresas está sometida al deber del secreto establecida en la ley de sociedades de capital

por lo tanto ni siquiera cuando las empresas reciben apoyo público esta información es pública este es el talante de la nueva gobernanza

actualizadas de estos fondos en google que en la página web del gobierno vasco y malo es la falta de información pero aún peor es la desinformación y vuelvo al caso de la caf en la caf se ha dicho que se ha utilizado el famoso fondo o la primera parte

de ese fondo de doscientos cincuenta millónes de euros que se ha prometido no es verdad se han utilizado cuarenta millónes del instituto vasco de finanzas

tampoco es verdad hasta la prensa cualquiera sabe que se ha hecho para mejorar

y no porque sea interesante para el país pero vayamos con la cuestión de la arbitrariedad

si nos ponemos a analizar las empresas apoyadas por el fondo ezten que está participado un ochenta por ciento por la spri nos encontramos con que hay empresas que reciben

a sus participaciones del cuatro por ciento y otras del cuarenta por ciento diez veces más o diez veces menos quién sabe debido a qué

que por supuesto imagino no paga sus impuestos en euskadi nos encontramos también oh sorpresa con que se ha apoyado a empresas en dificultades

que se nos ha dicho también que no es posible se ha apoyado en su día en dos mil doce a bikila se ha apoyado a alfa lan que ahora vuelve a estar en crisis

sin embargo se nos dice que eso no es posible con otras con unas sí con otras no

solamente entre dos mil trece y dos mil dieciséis los seis fondos exclusivamente públicos

que maneja la spri han perdido treinta y cuatro millónes de euros treinta y cuatro millónes de euros de ellos veintiuno millónes de euros los ha perdido el fondo ezten el fondo de ekarpen

perdió cuarenta y cinco millónes de euros con la cuestión de fagor y cegasa entre otras evidentemente esto nos hace replantearnos cuales son los criterios de inversión que maneja sgeic para tomar participaciones en unas y en otras no y nos encontramos con que sgeic en su página web establece como uno de los requisitos que el equipo directivo sea competente comprometido y profesional como por ejemplo el de alfa lan que se llevó crudo dos millónes y medio de euros después de vender parte de la empresa

en resumen entendemos desde nuestro grupo parlamentario que es preciso analizar las estrategias de inversión que está siguiendo el gobierno que es preciso analizar los resultados que están consiguiendo estos fondos no solamente los resultados financieros también los resultados en cuanto

real o no real hay que reestructurar los fondos existentes tenemos una multiplicidad de fondos donde parece que cada administración puede tener el suyo y así por ejemplo ezten participa en un cincuenta por ciento

de gipuzkoa que es quien toma las decisiones y ezten pone el dinero tenemos por ejemplo que regular

por los que se guían los comités de inversiones de estos fondos para incrementar la objetividad y la transparencia y tengo que decir aquí que esa mayor objetividad y transparencia irá en favor de quienes usan estos fondos que son las empresas vascas no en favor de este grupo parlamentario que hace las preguntas

el interés de la objetividad y la transparencia es para las empresas vascas para la economía vasca no para este grupo parlamentario

evaluar que parece que no es una obligación de este gobierno evaluar la eficacia de estos instrumentos en la consecución de sus objetivos laburbilduz

guztioi en los últimos tiempos meses

hemos vivido una auténtica ceremonia de la confusión en torno a los planes y objetivos del gobierno vasco en relación a los fondos de inversión públicos

el apoyo financiero y la inversión pública hacia el ámbito empresarial creo que estamos confundidos nosotros nuestro grupo

pero también están confusos los medios de comunicación la opinión pública y los propios componentes del tejido económico y empresarial de este país

decía que aproximadamente dos años hablando o dando el mismo nombre a cosas distintas y refiriéndose a la misma cosa con distintos nombres

decía que un fondo de inversión que había propuesto el lehendakari en marzo de dos mil dieciséis había pasado a mejor vida y no se había tenido nueva noticia cuando a finales de ese año se había presentado algo muy parecido que suponemos que es eso pero con otro nombre pero no era un fondo de inversión sino

a las empresas y es lógico está todo el mundo confundido porque el propio gobierno

y los planes y es importante saber de qué estamos hablando gaurko eztabaidak ez du agortzen gaia talde honek aurkeztu du interpelazio bat gobernuari zuzenean

sociedad de gestión de capital riesgo delakoarenpean dauden

nos encontramos ante la necesidad de afrontar una reorganización integral del sistema de fondos y sociedades de capital riesgo de las instituciones públicas vascas para hacer frente a la permanente fuga de empresas o al menos de centros de decisión de empresas para hacer frente también al enorme ciclo de desinversiones en el que está kutxabank para corregir los errores que en el pasado se han dado en la gestión de las empresas participadas por el gobierno vasco y para encajar en ese sistema de fondos y sociedades de capital riesgo el nuevo macrofondo que el gobierno quiere poner en marcha para eso es necesario evaluar

el grado de cumplimiento de sus objetivos de cada uno de los fondos y trazar un camino conjunto de definición

hablando de su número de su orientación de sus dotaciones económicas de su duración y también de la definición de sus comités de inversión y también de sus criterios eskerrik asko

presidenta egun on analizada por los socialistas la propuesta de elkarrekin podemos hemos presentado junto con el grupo nacionalistas vascos una enmienda a la totalidad en la que instamos al gobierno vasco a realizar tres acciones en concreto

y el instituto vasco de finanzas optimizando la implicación de las instituciones europeas en el desarrollo de estos instrumentos instamos también al gobierno vasco a estructurar el fondo de inversión de doscientos cincuenta millónes para que opere

con capacidad de desarrollo económico y con voluntad también de generación de empleo y en tercer lugar y no por ello menos importante instamos la revisión de los instrumentos financieros y los programas

con el fin de incrementar su efectividad en la consolidación del empleo presente y futuro garantizando el crédito a las pequeñas y medianas empresas e impulsando la inversión productiva en sectores estratégicos y sostenibles y hacemos esta propuesta en base a las siguientes consideraciones primero el plan de industrialización dos mil diecisiete dos mil veinte y los instrumentos

en el mismo fueron ya objeto de debate en la comisión de desarrollo económico e infraestructuras del pasado mes de octubre y allí consensuamos algunas propuestas de resolución que sin duda enriquecieron aquel plan y anualmente se ponía en ese plan se revisará el mismo

será objeto de modificación o de reorientación y los socialistas vascos consideramos que ya están implementados los mecanismos de transparencia y publicidad de los recursos públicos que se adjudican para atraer inversiones y capital privado

y con capital público privado y en su exposición señor becerra usted señalaba la diversidad de instrumentos de financiación y de programas así como los distintos objetivos

es decir que cada programa que cada fondo tiene un destino para un impulso concreto para un desarrollo concreto que cumple por tanto una función determinada

ha comportado inversiones o participaciones en empresas que siguen en activo en la actualidad el propio gobierno vasco cuando realizó la presentación de la compra del uno coma veinticuatro por ciento

ya señaló que ese fondo publico privado de doscientos cincuenta millónes de euros que pretende representa una nueva estrategia empresarial de adquisición de acciones cuyo objetivo es garantizar el crecimiento de la economía vasca y el arraigo de empresas vascas con potencialidad tecnológica y de internacionalización

una reordenación de los instrumentos financieros del gobierno vasco que con el objetivo de dar

que cuentan con un gran potencial económico internacional para favorecer su crecimiento e impulsar el arraigo de las compañías con carácter tractor y estratégico

es un reto un reto que busca la atención de inversores privados con objetivos diferentes a otros fondos que ya existen en la actualidad

es que entrando en el capital de empresas tractoras evitar que estas caigan en manos del capital extranjero y que el centro de decisión se pueda trasladar fuera del país vasco esta primera actuación se ha instrumentado a través de socade

finanzas a través del fondo social lo que no prejuzga

la fórmula definitiva de instrumentación del fondo de participaciones empresariales del gobierno vasco en el futuro habiéndose comprometido el ejecutivo vasco a definir este primer cuatrimestre los instrumentos financieros

con el fin de posibilitar ese impulso tan necesario a las empresas tractoras del país vasco y en otro orden del cosas todos los fondos o están directamente gestionados por sgeic o bien tienen firmados con esta empresa contratos de asesoramiento

presentan determinadas características informativas que restringen las mismas no lo ha señalado el señor becerra pero también es verdad que las decisiones de inversión del gobierno vasco

que son públicas y que en el caso de los fondos cien por ciento de capital público están sometidas

de o al menos control y seguimiento del tribunal vasco de cuentas y en todos los casos supervisados por la comisión nacional de valores y elkarrekin podemos

social corporativa porque así se lo respondió el propio gobierno vasco a una pregunta que hicieron ustedes

en los consejos de administración o en las juntas de accionistas de las empresas participadas el o la analista de inversiones que ha realizado el análisis del proyecto de inversión ustedes saben que en algunos casos atendiendo a circunstancias como la carga de trabajo entre los analistas de inversiones o dependiendo también de la relevancia de la empresa el representante o la representante puede ser la directora general o el director o un analista de inversiones o un analista diferente a quien ha realizado el primer análisis ustedes saben también porque así se lo respondieron por escrito que los representantes de

actúan siempre en beneficio de la empresa participada cumpliendo siempre las obligaciones legales de diligente administración lealtad y fidelidad en las juntas de accionistas los representantes de gestión de capital riesgo del país vasco actúan en defensa de los intereses de los fondos de capital riesgo gestionados por sgeic

directa y constante con los órganos de dirección de la sociedad que se celebran reuniones con carácter periódico entre todas las personas involucradas en el seguimiento y control de las empresas participadas

y se fijan en caso de necesidad directrices de actuación en las mismas ustedes saben también que se celebran reuniones con carácter periódico entre la dirección general de sgeic

en las que se tratan los asuntos relevantes o situaciones especiales de empresas participadas por los fondos gestionados por la sociedad elkarrekin podemos es conocedora a través del departamento de desarrollo económico e infraestructuras de la existencia con fecha de catorce de septiembre de dos mil diecisiete

a través de fondos públicos o publico privados de capital riesgo gestionadas por ustedes son también conocedores de los fondos de capital riesgo a los que está asociada la participación saben el municipio de la empresa participada el tanto por ciento de la participación tomado la fecha de toma de la participación los principales criterios adoptados para la toma de la participación la rentabilidad media anual de la participación la remuneración y el dividendo saben ustedes que seis empresas están participadas por el fondo ekintzaile que cuarenta y cuatro están participadas con basque

que una con lampar dos mil trece que otra con lampar dos mil catorce

que saben ustedes también que los criterios adoptados para la toma de participación han sido la promoción del emprendizaje y la rentabilidad financiero social del proyecto o bien también la consolidación del tejido empresarial y saben cada empresa en qué con qué criterio ha sido concebida su participación conocen también ustedes

de pérdidas patrimoniales conocen las inversiones realizadas por los fondos durante el ejercicio

es decir el volumen anual de capital dedicado a la toma de aportaciones y el volumen anual de capital aportado por participes en ese mismo periodo

no vemos la falta de transparencia ni la falta o desconocimiento o desinformación de la que usted hablaba señor becerra sobre esos fondos sobre cómo han operado los comités de inversiones sobre cuáles han sido las decisiones de aportación por lo que no nos parece necesario introducir ninguna variable por el momento en cuanto a la regulación

que evalúan la solicitudes recibidas por los fondos y las sociedades de capital riesgo y lo digo porque ustedes en su intervención y en la exposición por escrito de su iniciativa hablan de riesgos de que no resulta en ningún caso constatable de que la regulación legal existente ha determinado reglas de juego que se desconocen bueno pues nosotros no lo vemos así no vemos no hablamos de inconveniencias ni de riesgos

las herramientas económicas y financieras son evaluadas todos los años y se hacen mejoras que son visibles además a través de las convocatorias públicas que se realizan y estas convocatorias van modificándose en la medida que las revisiones

esas modificaciones en el plan se ve claramente en el plan de industrialización se ve claramente que los instrumentos de financiación que se ponen a disposición de la industria en ese periodo de dos mil diecisiete dos mil veinte en este caso existen finalidades diferentes

quiénes son los responsables el uso principal de esos fondos y la estrategia que en definitiva y a nuestro modo de ver no existe un problema de unidad de criterio en la aplicación de los fondos lo más importante a nuestro modo de ver es que la aplicación de esos fondos sea efectiva que sea eficaz

de un empleo digno y de calidad y sí esto no se consigue se revisa la situación

y los instrumentos de financiación que además están contemplados en el propio desarrollo del plan nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

los instrumentos financieros son herramientas fundamentales para el desarrollo y aplicación

y sus orientaciones y sus objetivos se determinan con los diferentes planes de gobierno

los que tienen consideración de ayudas públicas que en general son un soporte de la política de incentivos y que responden a la tendencia que últimamente promueve la unión europea de sustituir las subvenciones sin perder el efecto incentivador aquí podrían estar los programas gauzatu o bideratu y el otro bloque son

cuyo objetivo es dinamizar o complementar al sector financiero en el sentido de las políticas públicas que se vayan estableciendo en cada momento y que en ningún caso se consideran ayudas públicas

aquí tenemos varias tipologías unas pueden ser iniciativas gestionadas mediante convenios suscritos con el conjunto de entidades financieras o con elkargi o el mismo convenio

ahí está nuestro primer punto en nuestra enmienda

pidiendo que estos instrumentos apoyen las pymes la gestión en este caso la realizan desde los órganos de gobierno de cada una de las entidades financieras

todas se rigen por criterios privados en sus tomas de decisiones y están sometidas al control del banco de españa y la cnmv

que gestiona diferentes bastantes fondos de inversión públicos o públicos privados que se alinean

los órganos de gobierno están claramente determinados en este caso en cuanto a criterios procedimiento constitución y responsabilidad

tras la didáctica vuelvo a que el debate es tan reiterativo

señor becerra coincide con la propuesta de resolución cuatro de podemos en el debate del plan de industrialización y la tercera era una travestida de la siete que presentó en aquel debate también presentaban otra la tres

y curiosamente en el debate se aprobó por unanimidad por eso

en nuestra enmienda eso supone que si la aprobamos en octubre

bien lo mismo que la trajimos por la misma razón se supondría que la suya la rechazaremos pero como la ha transccionado y la ha convertido en otra cosa pues perfecto

en cualquier caso nosotros entendemos pedimos también que se estructure ese fondo

en cualquier caso recordemos que ese fondo de doscientos cincuenta millónes de euros se define con objetivo

y dice que es garantizar el crecimiento y el arraigo de empresas vascas con potencialidad tecnológica y presencia en los mercados globales es decir no es genérico tiene

ya le he explicado la variedad de fondos que se aplican en apoyar las inversiones de las empresas vascas público privados mixtos dedicados al emprendimiento generalistas

logikoena dirudi sorrera babesten jarraitzen qué ganamos porque por ejemplo

composición se acojan en su seno el próximo a desaparecer el fondo sustapen

es confundir es pasar dinero a fondos con otros objetivos y otras filosofías no sé es como fusionar vamos a fusionar spri y lanbide porque los dos tienen un objetivo mayoritario que es mejorar el país

en la transacción cambia pero lo que piden en la transacción

luego hablaremos de eso en cuanto a composición y funcionamiento del comité de inversiones de cada fondo y me refiero lógicamente a los gestionados por la sociedad de capital riesgo del país vasco con mayoría pública

es pública la página web se puede entrar desde google pero se puede entrar directamente

las comisiones ejecutivas delegadas que se constituyen en los comités de inversión de cada fondo

le ha listado todas las preguntas y solicitudes de información que les han dado

si partimos de lo que usted ha dicho al principio que es todo opaco oculto que a mí el principio parecía la sensación de que estábamos en la cueva de mordor pues hombre es mucho más transparente de lo que parece porque realmente ustedes saben mucho no solo por lo que miran por lo que escuchan sino por lo que le preguntan y le responden y por lo que está en la página web

en sí mismo un contrasentido con el propio plan si este tiene el plan múltiples objetivos para los que diseña diferentes instrumentos subvencionales de inversión de apoyo variados no parece lo más lógico

no sé las ayudas para intensificar la atracción de inversión del exterior generadora de empleo a través de invest seguro que maneja criterios y es lógico que maneje criterios de priorización diferentes

para las capacidades de innovación no tecnológica respecto a la publicidad de estos criterios en los programas subvencionales lo son sin duda

si son ayudas públicas derivadas de unos decretos informados públicamente

y que contienen todos los requisitos para acceder a las ayudas y las puntuaciones que se otorgan en función de los objetivos que se pretendan alcanzar otra cosa es

si usted lee detenidamente el plan observará en la página cuarenta y seis se lo digo para que lo señale con un post it se definen sus objetivos estratégicos que no son otros

reducir un veinte por ciento la tasa de pobreza y que la industria alcance

y por si fuera poco en la páginas sesenta y cuatro se establece un método de seguimiento y evaluación del plan

anuales para ir evaluando su marcha frente a los objetivos previstos

es decir cada proyecto se debe evaluar en función de su aportación a los objetivos previstos en el plan empleo pib tasa de pobreza y lógicamente además deberá cumplir la normativa vigente en la materia la fiscal la laboral y la medioambiental

nuevos valores a considerar en la priorización de proyectos supondría un fraude una modificación global del plan de industrialización

pero le añade la valorización medioambiental que entonces no la hizo se acuerda usted que el debate del plan de industrialización lo hicimos el dieciséis de octubre

el veinte de octubre cuatro días después en cuatro días volvió

ustedes pueden cambiar sus enmiendas entre el dieciséis y el veinte de octubre si así lo desean

los objetivos de un plan que fue objeto de un debate monográfico y una aprobación mayoritaria de este parlamento gracias

muchas gracias señora presidenta nosotros no hicimos enmienda porque la propuesta ya la habíamos debatido hace tres meses en el plan de industria entonces

por lo tanto entendíamos que no hacía falta hacer una enmienda en cualquier caso le diré que es cuando menos contradictorio lo que están haciendo y lo que están planteando

que no se cree el fondo de doscientos cincuenta millónes solo que planteaban incluso en esta iniciativa que nos han traído hoy porque decían que se subsumiera con los otros fondos que ya existen previstos en el plan de industria

luego firma una transacción en la que dice que hay que buscar un acuerdo para crear ese plan o sea usted pasa de plantear que no hay que crear el plan

para terminar diciendo que no hay que crear el plan porque en el punto cuatro

si hay que unificar los criterios hay que tener solo un fondo porque claro

plantea que no se cree luego plantea que se cree para terminar planteando que no se cree y yo llega un momento en el que me pierdo y yo entiendo que la crítica al gobierno que yo también le voy a criticar un poco no se crea usted

el liberal soy yo se supone que el de izquierdas es usted

pues apaga y vámonos porque es lo que ha hecho usted aquí el gobierno vasco nos decía que no se podía apoyar empresas en crisis y ha apoyado

qué quiere que le diga o que usted me hable de la rentabilidad de los fondos públicos de inversión

trece y el diecisiete por ciento para obtener beneficios de sus inversiones con lo que es un fondo público en el que

es que se ha perdido dinero en este fondo y en este fondo estamos hablando de fondos públicos

y le repito que el liberal soy yo pero claro es que una cosa es ser liberal y otra es ser

que hay que ser en esta vida cuando nosotros y todos estamos viendo como todos los países ayudan a sus empresas incluso hacen instrumentos

el capital de esas empresas o el domicilio social de esas empresas por lo tanto le digo que no estamos de acuerdo segundo no estoy de acuerdo para nada con que para crear ese fondo el gobierno vasco tenga que llegar a un acuerdo con los agentes socioeconómicos

primero porque los agentes socioeconómicos pueden tener intereses contrapuestos

y me voy a explicar puede ser contrapuesto el de los empresarios que quieren vender las empresas y el gobierno vasco lo que quiere es que a lo mejor que se retenga aquí el capital

que ejemplos tenemos de todo esta vida y cuando estamos hablando de un fondo público privado pero para en fin

de empresas vascas para que continúen en el país vasco pues no parece lo más razonable llegar a acuerdos previos para crear ese fondo

que son los agentes socioeconómicos y yo no me extender mucho más porque si hay otra cosa señora corcuera en fin la compra de acciones del gobierno vasco a kutxabank

a kutxabank en aras a ese famoso fondo

y estamos hablando de noviembre del diecisiete hace dos meses

que ustedes mismos reconocen en el punto dos de su transacción que se la voy a votar porque estoy de acuerdo en que se cree el fondo que si hay que crear el fondo no ha sido con cargo a ese fondo con lo que se han comprado esas acciones de kutxabank ni siquiera con los criterios

que haya decidido el gobierno vasco y tampoco es para fortalecer el capital digamos público en una empresa muy importante del país vasco porque lo que hace el gobierno vasco sustituir

estamos diciendo que kutxabank es una empresa privada cuando el cien por cien del capital pertenecen a las fundaciones

que todos conocemos pues nos estaremos haciendo trampas en el solitario

público y privado se entendía que dentro de ese privado uno de los importantes sería kutxabank o vamos a crear el fondo para sustituir a kutxabank

o para que kutxabank tenga más liquidez ahora que nosotros hemos tenido en fin el superávit que hemos tenido al finalizar esta año entendemos que

está mejor destinado a otras funciones y por eso nosotros vamos a votar a favor

de la enmienda transaccional que presenta el gobierno y tengo que decir que es que en el plan de industria porque aquí cuando se habla de evaluación es que en el plan de industria

ya está prevista que es lo único

volver a reiterarlo ahora si el representante de bildu tiene una moción

supongo que volveremos a hablar de lo mismo dentro de un mes eskerrik asko damborenea jauna

tratan de confundir el debate deliberadamente para huir

y claro que estos instrumentos financieros tienen una función en el plan de industrialización también lo tiene en el de internacionalización

son instrumentos financieros del gobierno genéricos no solo para la industria

entonces evaluar el plan de industrialización es una cosa y evaluar el resultado de estos fondos es diferente por qué queremos evaluar la efectividad de estos fondos para ver si necesitamos más fondos o no en ningún momento de nuestra proposición inicial se dijo que no quisiéramos el fondo de doscientos cincuenta millónes lo que decíamos explícitamente es

de manera que los fondos ya existentes pudieran puedan asumir las funciones y los objetivos que se plantean en este fondo nuevo que se ha planteado

el fondo sino que se evalúe su necesidad y su coordinación con los fondos ya existentes porque ahora mismo tenemos una panoplia de fondos

que participa en un cincuenta por ciento en el fondo seed gipuzkoa

para decidir la diputación de gipuzkoa en su propio txokito a quien apoya y a quien no y es el mismo fondo

no todos los fondos que tenemos no todos los fondos que tenemos son necesariamente los que deberíamos de tener

que va a tener una nueva orientación nos dice el señor tellería que va a tener un objetivo cuál se ha dicho el arraigo de las empresas ese ya lo tiene algún otro también pero lo primero que han hecho ustedes es

y después ya configuraremos el fondo provisionalmente lo hemos hecho a través de socade pero bueno esto igual puede cambiar o sea ustedes primero comparar las acciones y luego lo configuran

realmente no parece muy serio desde un punto de vista de la gestión empresarial hay un fondo ya

es público privado mayoritariamente de kutxabank este fondo ekarpen plantea inversiones de entre diez y cuarenta millónes de euros

o prestamos participativos y que en empresas beneficiarias que tengan un carácter tractor como tiene la caf en sectores innovadores estratégicos como es la caf y con potencial de crecimiento como es la caf

porque ya estaban en manos de kutxabank si el gobierno quiere garantizar el arraigo

la participación de ekarpen y se acabó el problema a que están jugando ustedes

realmente a lo mejor es necesario crear ese fondo pero a lo mejor no y lo único que décimo en nuestra transaccional es que se estudie y que además se analice eso

dicen ustedes que los criterios de decisión son transparentes bien

pues para conocer los criterios de decisión vamos mal hemos conocido las empresas que están apoyadas por las cuentas anuales que se publican y hemos tenido que hacer dos recursos de amparo a la mesa para que el departamento de desarrollo económico nos dé la información que ustedes dicen que tan alegremente nos ha dado y estamos en vías de presentar otro tercer recurso de amparo porque no nos da la información que pedimos

y por último le tendría que decir al señor damborenea que yo no he hablado de rentabilidad financiera

y yo no he hablado de la rentabilidad financiera de la rentabilidad para el tejido empresarial y económico que es lo que habitualmente en la izquierda denominamos la rentabilidad social

y por supuesto que habrá fondos que tengan que perder dinero y eso yo no lo pongo en cuestión al contrario yo sí entiendo a diferencia del portavoz

pues no a lo mejor hay que invertir dinero y perder dinero en esas empresas porque la rentabilidad social

es precisamente que se pierda dinero en esas empresas no lo pongo en cuestión lo que pongo en cuestión es

en la práctica se está haciendo y sin embargo se niega muchas gracias eskerrik asko becerra jauna

eguerdi on berriro yo pediría que no se nos hiciera trampa en los debates por un lado

se aprobó en su momento este grupo se posición en contra este grupo no se siente identificado con ese plan porque le parece insuficiente por muchas razones que en su momento expusimos se puede estar a favor o en contra del plan pero lo que no se puede pretender que porque se ha aprobado un plan de industrialización y

no se pueden presentar ningún tipo de propuestas que tengan relación con el modelo industrial porque entonces estaríamos mutilando el debate y la capacidad de esta cámara

de discutir y hacer contraposición de propuestas nuestro grupo siempre ha estado a favor

la constitución de un fondo para la inversión y la toma de participaciones en empresas estratégicas y como tiene nuestro grupo eh bildu tiene una vida relativamente corta desde el año dos mil doce que se presentó por primera vez a unas

desde que presentamos al primer programa ya traíamos la propuesta de constituir un fondo y en dos mil dieciséis

de constituir un fondo tampoco éramos especialmente originales se ha hablado muchas veces de ese tema incluso en esta cámara en el año

no del último sino del anterior ya se aprobó una resolución que se pedía constituir un fondo de inversión en empresas industriales luego el partido nacionalista vasco lo recogió en su programa está en el acuerdo de gobierno si el problema no es que estemos

del fondo nosotros estamos a favor el problema es ver si de una vez por todas se materializa este fondo

mutante en boca de los diferentes portavoces

de las características de la consideración jurídica porque no es lo mismo un fondo público que uno público privado que uno privado público como parece ser

lo privado que lo público que no es lo mismo que un fondo soberano o que un fondo digamos controlado fundamentalmente desde el ámbito de lo público por tanto que no se hagan lecturas retorcidas también sobre lo que se propone en esta transaccional que en ningún momento se cuestiona

que se defina y que no que se llegue a un acuerdo con los agentes socioeconómicos que se busque el acuerdo porque llegar a acuerdos no se puede exigir porque no está en manos del gobierno

tiene que informar tiene que escuchar la contrapropuesta tiene que dialogar y luego podrá llegar a un acuerdo o no

y con otros no pero es que si no se empieza el proceso si no se hace una oferta si no se expone a los agentes y a la sociedad lo que se quiere hacer

señor damborenea decía que en noviembre del año dos mil diecisiete el fondo era para dos mil diecinueve y ahora nos dicen que los cuatro primeros meses es decir la mutación es permanente en cuanto a la esencia en cuanto a los tiempos

es la dotación económica ya veremos si no nos encontramos con alguna sorpresa

de fondos y sociedades de capital riesgo va a afectar al resto va a afectar al resto porque los fondos características específicas y algunos de ellos tienen unas muy parecidas

del conjunto del ecosistema de fondos y de sociedades de capital riesgo porque evidentemente van a ser alteradas

subyacentes que nos obligan realmente a modernizar y a evaluar si estamos respondiendo adecuadamente a la realidad cambiante de nuestra economía y a realidades como decía antes de pérdida de centros de decisión o

por parte de kutxabank y entendemos que por ejemplo sí vamos a los fondos nos encontramos con un fondo lampar que no funciona o no funciona lo suficientemente bien como antes he expuesto

con un seed gipuzkoa que es un poco una anomalía porque tiene un carácter territorial

a la tesis del señor becerra en el sentido de que sí estamos a favor luego otra cosa es que se diga que no se puede y luego se esté haciendo luego hay unos que pueden invertir en las sociedades que no están en bolsa vamos a crear un nuevo instrumento para invertir en las sociedades que están en bolsa unos invierten en tecnológicas otros en fases de desarrollo

vamos a analizar si contamos con los instrumentos adecuados cómo han funcionado los existentes

nada que condicione de antemano el que la elección o que el diseño final vaya en una dirección o en otra lo que pedimos es algo

que se haga un diseño integral y que se haga mediante un diálogo y de forma transparente con el conjunto de los agentes sociales pero desde luego lo que sí tenemos claro

un fondo con vocación de permanencia porque muchos de estos fondos además tienen fecha de entrada y de salida en las empresas un fondo con vocación de permanencia y un fondo con vocación de asentar el arraigo de las empresas industriales de este país y un fondo además que creemos que debería ser

casanova para los socialistas vascos lo importante no es tanto racionalizar la estructura de los fondos y sociedades en los que el gobierno participa como la revisión periódica de los instrumentos de financiación para hacerlos más eficaces en la mejora competitiva de las empresas vascas y siempre buscando

y para esos proyectos estratégicos y tractores que pretendemos que tengan arraigo en euskadi

se mantienen activos y en aquellos en los que se va recuperando el dinero van e irán despareciendo como es el caso de sustapen que aquí ya se ha comentado que se liquidará

año la inversión industrial debe seguir creciendo para no perder oportunidades de mejoras

y por eso las herramientas son evaluadas y se analizan todos los años modificándose por ello también las convocatorias como he señalado

los fondos de inversión de participaciones industriales son cada vez más necesarios porque responden a las orientaciones a las líneas de actuación y a los programas de la política industrial que vamos aprobando para cada periodo y porque se hace necesario también participar en aquellas empresas que quieren crecer

y que requieren entonces la intervención de la administración y entre las principales conclusiones de la evaluación del plan de industrialización dos mil catorce dos mil dieciséis

que ver con la cuestión económica y me parece que además es importante destacarla y dice así como acción especialmente destacables de las veinte líneas de actuación previstas de desarrollo están

el desarrollo del programa hazi de apoyo financiero a pymes la puesta en marcha y desarrollo del fondo lampar

en el capital de empresas estratégicas del país por tanto la financiación

es un elemento clave para la industria vasca y de ahí

evaluada diseñada revisada y modificada en función de las necesidades

y por eso ante la propuesta que hacia elkarrekin podemos respecto a ese resumen en

o posibles conveniencias y en previsión de no se sabe muy bien qué a los socialistas vasco no parece muchos más importante mucho más interesante poner en relieve y en valor

que se potencie la financiación para pymes que se busque la optimización y la eficacia también de otras administraciones públicas que intervienen como son las instituciones europeas que respecto a ese fondo de inversión de doscientos cincuenta millónes

en el desarrollo económico y en la generación de empleo y por eso también proponemos que se revisen esos programas de ayuda esos instrumentos financieros de esa política industrial

fundamentalmente porque hay un objetivo claro y es que seamos efectivos que sean efectivos esos fondos esas ayudas

el crédito a las pymes impulsando la inversión productiva en sectores estratégicos y sostenibles que en definitiva son los sectores de futuro

eguerdi on guztioi no me diga que estoy falseando el debate el origen de esta pnl del señor becerra tiene tres

el veinte de octubre que son tres de las propuestas que no se le aprobaron en el plan de industrialización luego es una reiteración del plan de industrialización en su origen de la propuesta y por tanto yo la trabajo desde esa perspectiva y lo único que digo es un plan que se ha mandado se ha hecho público

han emitido informes hemos dedicado un monográfico en el parlamento con propuestas de resolución y vamos a venir por una pnl porque no me han aprobado esto

por ahí no y no me he inventado yo que es una reiteración del plan

otra cosa es que en la transacción hombre le han dado una vueltita

porque la primera propuesta de su transacción el parlamento insta al gobierno a que realice y presente una evaluación sobre la actividad de los fondos es exactamente la propuesta de resolución aprobada número cinco que es incluso más completa porque dice el parlamento insta al gobierno a revisar los instrumentos financieros y los programas de ayuda a las industrias en colaboración con los agentes económicos y sociales

y nosotros en el plan ya lo dijimos y está aprobado por unanimidad es decir e incluso en la transacción es una reiteración de aquel debate vale

mañana hay una interpelación hay una comparecencia el martes de la sailburu tendremos una moción ustedes seguirán diciendo una cosa y nosotros la misma

pues esa perspectiva tiene a ver si somos capaces de convencernos un poquito los unos a los otros de avanzar en este debate sobre los fondos porque

pero es que además sí que hay bastantes fondos pero saben a qué se dedica cada uno este es público este es público privado este es para emprendimiento este es para empresas maduras

ekarpen sabe por qué no entra en caf señor becerra usted lo sabe

y usted lo sabe usted dice medias verdades usted ha dicho por ejemplo que el portavoz nacionalista

que caigan lo dije seguro o lo ha sacado de contexto le invito

esa frase y yo estaré dispuesto a reconocerlo pero en el contexto completo en el que lo pude decir porque se ve

eso es manipular la información y luego saben tanto saben que lampar es para sociedades anónimas laborales sabes que solo hay dos y por qué solo hay dos

que tenga esa capacidad y tampoco ningún fondo ha entrado en empresas en crisis

es muy distinto es muy distinto es que señor becerra venga usted a decir las cosas de verdad no se convierta tan rápidamente en un político a la vieja usanza a ver sea del nuevo estilo de política que ustedes tanto propugnan digan las cosas como son no diga trocitos de las cosas

es verdad está usted manipulando las cosas está usted manipulando las cosas está usted diciendo medias verdades pero bueno en cualquier caso ustedes han reiterado de nuevo prácticamente el plan de industrialización y el plan de industrialización está aprobado y lo mismo que dicen no es que las ayudas

en su transacción que se hagan públicos los criterios de ayudas contempladas

siguen insistiendo en el tema si quieren salgamos de ahí cuando demos por aprobado definitivamente el plan de industrialización y empecemos a trabajar otras cosas

por mayoría parlamentaria y en eso estamos eskerrik asko

y usted sabe que eso no es cierto usted no ha pedido que se evalúe nunca nunca

y en la enmienda que plantean exactamente lo mismo y cuando se dice que los criterios de concesión de ayudas contempladas en el plan de industrialización sean los mismos

y todo lo demás en fin lo que usted quiera nos dice

pero el que ha hablado de pérdidas de dinero del fondo ha sido usted

como crítica no porque no haya cumplido las funciones socioeconómicas que tenía encomendadas sino porque ha perdido dinero

y yo le he dicho que en fin que me extrañaba viniendo de usted que hiciera esa crítica

de lo que hemos votado hace tres meses en el plan de industria

a que se haga la primera evaluación y tampoco sé porqué algunos se sorprenden de que alguno de los fondos desaparezca si se hace la evaluación y se ve que alguno de los fondos no ha cumplido los objetivos previstos pues lo lógico será quitarlo o cambiarlo o modificarlo

pero eso es para lo que estamos y por último yo vamos a ver lo de las ayudas a las empresas en crisis es que la consejera y el gobierno y todos les dicen que es que es ilegal

y que no se puede y que no se puede pero ustedes están a favor